esta apuesta contra la violencia machista a todos los niveles se trata de un trabajo conjunto

es fundamental la coordinación entre distintos agentes para lograr erradicar esta violencia contra las mujeres que desgraciadamente todavía existe en nuestra sociedad es por ello que queremos formular a la consejera de empleo y políticas sociales la siguiente pregunta qué aportación hace el departamento de empleo y políticas sociales
a la labor que realiza el gobierno vasco para la atención de la violencia machista eskerrik asko eskerrik asko ipiñazar

mahaiburu andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideak egun on guztioi la violencia contra las mujeres tiene lamentablemente un carácter estructural

y las mujeres asesinadas en nuestra comunidad autónoma durante los últimos años no son sino la punta del iceberg de la desigualdad de nuestra sociedad y ahora más que nunca debemos poner pie en pared frente al negacionismo de la ultraderecha machista

además de una absoluta condena tenemos que subrayar que euskadi solo podrá avanzar como sociedad cohesionada y desarrollada si logramos acabar con esta desigualdad para hacer frente a la violencia contra las mujeres es necesario intensificar una respuesta

que dé una atención personalizada sea cual sea la puerta de entrada de las mujeres al sistema de protección contra la violencia machista la respuesta debe ser única tenemos que seguir intensificando una ayuda coordinada e integral con la implicación proactiva del departamento de empleo y políticas sociales

así como de las diputaciones forales y los ayuntamientos gure sailean indarkeriaren biktima diren emakumeentzako informazio eta arreta zerbitzua

eta diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez desde dos mil seis con la puesta en marcha del satevi teléfono de atención a estas víctimas

y su pionero convenio con el teléfono estatal dieciséis

contamos con un equipo de profesionales especializadas al frente de este servicio inmediato anónimo confidencial y gratuito

el satevi está disponible veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días al año estamos preparando nuevas acciones de sensibilización las mujeres que sufren violencia a menudo se sientes desamparadas sin saber a dónde acudir

diez millónes de euros anuales en favor de las víctimas de violencia machista

desde las oficinas de lanbide ofrecemos un servicio de orientación socio laboral específico para las mujeres víctimas de violencia machista a través de la figura tutora de violencia de género ciento treinta profesionales atienden a estas mujeres en dos mil veinte vamos a seguir reforzando la formación en lanbide para la detección y prevención de posibles situaciones de violencia contra las mujeres además con la rgi se trata de atender las necesidades básicas de las mujeres víctimas así como la de sus hijos e hijas

víctimas han recibido la renta de garantía de ingresos también hemos reeditado la guía qué hacer ante la violencia contra las mujeres

y también quiero destacar la gestión que desde nuestro departamento hacemos en relación a la prestación económica de pago único con un importe previsto para el año dos mil veinte

una ayuda destinada a las mujeres víctimas de violencia de género que necesitan un apoyo económico para poder iniciar una vida independiente autónoma y lejos de un agresor es uno de los objetivos prioritarios de este país

pues bueno señora tapia que usted considere un problema privado que doscientos trabajadores del ámbito industrial en dos comarcas muy afectadas por el desempleo y la

cuándo decide el gobierno vasco intervenir un problema cuando los trabajadores llevan semanas acampados en la puerta de una empresa calentándose con maderas en bidones o cuando la policía entra en una fábrica porque parece que el único departamento que se ha movido en este caso es el departamento y seguridad ni trabajo ni industria han correspondido en el momento oportuno ustedes y ya sé que es un tema serio pero siempre me gusta una nota de humor recuerdan aquella frase

siempre reactivos nunca proactivos nunca responden a los problemas en el momento adecuado y cuando aparecen siempre es tarde y a petición de alguna de las partes

proactivo que empiece a actuar en el momento oportuno ustedes están llegando tarde y aquí hay un papel del gobierno en ambos dos casos tanto en cables y alambres

ustedes intervinieron en su momento ustedes tienen la labor de

vascas principales y ponerse en contacto cuando detecten problemas no digo que intervengan como se decía ayer

o si tienen que vender la tonelada de cables a un precio u otro pero cuando una empresa con más de cien trabajadores está a punto de cerrar

y como le digo siempre no pueden dar la garantía de mantener abiertas todas y cada una de las empresas porque eso sería generar falsas expectativas ustedes no tienen esa obligación

de planes de participación de los trabajadores en la propiedad de búsqueda de nuevos inversores de apoyos a nuevas inversiones

cuando las situaciones están deterioradas hasta el extremo cuando estamos ya en una situación de concurso muy avanzada sino desde el momento en que se detecta el problema

a que gestione de otra manera porque está llevando las cosas muy mal y si ahí

con su actitud la situación y a generar todavía más tensión eskerrik asko casanova jauna

casanova jauna ba zure humorez erantzun egingo dizut como parece que en euskera no me ha entendido

tenemos o no tenemos herramientas tenemos o no tenemos protocolo porque si tenemos toda una panoplia de herramientas efectivamente ahí están y las estamos trabajando y usted me ha dicho han

y además dado que es una situación en dos empresas privadas las propias empresas han propuesto una posible solución una alternativa a los trabajadores

de acuerdo hay otras alternativas con las que estamos trabajando en este momento qué tenemos que buscar

empleo para esas personas pero para que esas empresas ambas dos vicinay y caesa

eso no es sencillo porque depende del mercado también como usted bien sabe pero

de poner a disposición de todas y cada una de las empresas porque hay más en dificultades además de estas dos hay más empresas en dificultades todas las herramientas de las que disponemos todas y cada una de las herramientas pero siempre y usted lo sabe bien tiene que ser con acuerdo de los trabajadores

y desde luego con la participación de los principales accionistas de cada una de las empresas y esas son las premisas con las cuales podemos actuar ninguna otra y eso es como actuamos buscando alternativas e insisto no en el momento en el que aparece en los medios de comunicación o en el que está en la calle no muchísimo antes

eso sí sin hacer mucho ruido porque las cosas se solucionan desde luego poniendo sobre la mesa diferentes alternativas de las cuales disponemos y que se han puesto e insisto ambas empresas batz y vicinay como responsables de la adquisición

han puesto sobre la mesa una alternativa que no era la ideal probablemente pero una alternativa que se ha negado habrá que buscar otras formas de hacer pero no se puede negar

ha habido por parte privada y hay por la parte privada y por la parte del gobierno si usted no lo quiere ver eso es otro tema si quiere se lo cuento en inglés para que así me entienda mejor eskerrik asko

konplexua duen diputatuen kongresu bat una fragmentación complicada pero no

ahora mismo hay una posibilidad de formar un gobierno progresista en el estado que ha tomado nota por un lado del descontento

tener una extrema derecha fuerte y en subida no nos cabe duda de que el acuerdo al que han llegado partido socialista y unidas podemos en el estado es bueno para euskadi en primer lugar porque se da

pero también sin duda porque los acuerdos programáticos nos van a servir para abordar

de la reforma laboral que afecta a muchísimos trabajadores en euskadi y la ley mordaza el impulso del pacto de estado contra la violencia machista

hablamos de un gobierno que además hace una apuesta decidida por el diálogo

viable la solución de un conflicto territorial enquistado tensionado

y además el diálogo también es el camino por ejemplo para avanzar en la actualización del estatuto de gernika avanzar en el respeto

así como abordar sin estridencias políticas ni amenazas políticas de ningún gobierno la relación de euskadi con el estado diálogo y soluciones a quién le puede parecer mal

handiena por lo tanto en la medida en que sin ninguna duda

por un lado a llevar a cabo políticas que hagan inservible el discurso de odio a la extrema derecha y por otro

creo que ninguna fuerza vasca puede permitirse el lujo de votar junto a la extrema derecha para que continúe el bloqueo

y también señor lehendakari desde elkarrekin podemos esperamos

contribuyan a hacer de euskadi punta de lanza contra la extrema derecha defendiendo y asegurando derechos

asegurando que nadie se quede atrás y las personas se sientan representadas por unas instituciones que trabajan por el bienestar de la mayoría
y no por intereses ni propios ni partidistas eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

señor martínez ha hecho usted referencia a dos

una es la relativa a la derecha extremada o a la extrema derecha otra la complejidad

los cinco pasos como son acordar un programa garantizar la estabilidad superar la investidura garantizar también la gobernabilidad y en último extremo también aprobar los presupuestos soy partidario de mirar hacia delante y lo voy a hacer también hoy

en relación a lo que también usted ha dicho han demostrado que con voluntad y discreción realismo y responsabilidad es posible entenderse y llegar a acuerdos aunque estos acuerdos no puedan gustar a todos queda mucho por hacer pero es evidente

es imprescindible generar un nuevo clima de confianza es imprescindible también asentar las relaciones sobre un programa de compromisos y demostrar

espero y deseo que el primer acuerdo sea capaz de integrar las sensibilidades suficientes espero que afronte el problema de la territorialidad en el estado con realismo y aplicando los principios de la política que asuma también como tareas pendientes de inmediata ejecución

la inversión en infraestructuras el plan de garantía juvenil el cambio en profundidad de la reforma laboral la garantía de las pensiones

en el caso de euskadi que usted también en su última parte de la intervención hacía mención yo espero y deseo que este nuevo tiempo tenga al menos dos efectos positivos primero que prime el realismo y la coherencia

y segundo que el gobierno español cumpla sus compromisos que priorice el cumplimiento íntegro del estatuto de gernika retomando el calendario y el plan de trabajo

no hay tiempo que perder para garantizar la gobernabilidad y ofrecer respuestas a los retos económicos sociales territoriales y políticos que afrontamos
nuestra disposición en ese sentido también es absoluta eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera

egun on señora consejera antes de ayer miércoles cuando compareció en la comisión de presupuestos para la presentación de las cuentas del departamento de trabajo y justicia que usted dirige

por la mejora tan sustancial que durante esta legislatura se ha impulsado de los servicio de colaboración con la justicia sobre todo

por un lado por lo que son las medidas alternativas resocializadoras y reeducadoras reintegradoras en la sociedad y por otro lado por la atención integral de las víctimas de delitos le decía

hoy en día existe una realidad social que tiene una especial incidencia en la administración de justicia y que es ineludible para cuales quiera poderes públicos

machista y me alegro que hoy sea la segunda vez que vayamos a hablar de este tema con esa realidad negacionista que se nos está intentando imponer

que acaba de llegar al congreso señora consejera es indudable que uno de los fenómenos más insoportables que se dan en nuestra sociedad en una sociedad decente

o la violencia contra la mujer que representa uno de los síntomas más evidentes y claros de la desigualdad que existe en nuestra sociedad entre hombres y mujeres la idea de la supremacía del hombre sobre la mujer

la dignidad la igualdad la seguridad y la no discriminación durante mucho tiempo la violencia de género ha sido una realidad oculta

se trataba a menudo como una circunstancia que se daba en el terreno de lo privado algo que sucede todavía en otros países la concienciación de la mujeres y su movilización a lo largo de las últimas décadas han conseguido

esté adoptando posiciones mucho más sensibles y de rechazo frontal con el problema y en esa línea tenemos que seguir las instituciones de nuestro estado de derecho

a la violencia machista de una manera coordinada e integral el pacto de estado contra la violencia de género es un ejemplo de la línea a seguir para acabar con esta lacra

en base a lo que dicta la ley cuatro barra dos mil quince del estatuto de la víctima del delito que establece entre otras cuestiones el acompañamiento a las víctimas en los procedimientos judiciales las víctimas de violencia de género son víctimas sobre las que concurren unas especiales circunstancias

sociales anímicas y de especial vulnerabilidad que hay que tener en cuenta la atención especializada y personalizada a las víctimas es una necesidad que ustedes han asumido y afrontado

una atención que por cierto señora consejera es apreciada por diversos operadores jurídicos sin ir más lejos el próximo lunes dentro de tres días

fiscal superior jefe del país vasco en la presentación de la memoria de la fiscalía del ejercicio dos mil dieciocho en ella señora consejera como muy bien sabe la fiscalía hace un reconocimiento expreso

esa asistencia integral coordinada y especializada que realizan para dar respuestas a las necesidades específicas que tienen las víctimas en el ámbito jurídico psicológico y social

ustedes han puesto en marcha según nos dijo en su comparecencia un programa piloto que viene a cubrir el acompañamiento integral a víctimas de violencia de género el programa zurekin

cuáles son los objetivos y las características del proyecto piloto zurekin y cuál es su proyección futura

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideak egun on guztioi gracia señora castelo requiere información precisa sobre el proyecto
piloto zurekin que estamos impulsando desde el departamento de trabajo y justicia

tiene su base en dos motivos fundamentales uno como usted ha dicho la responsabilidad competencial que nos otorga la legislación vigente y el decreto de estructura del departamento el otro motivo es el compromiso del gobierno vasco en la lucha contra la violencia de género

la situación que le ha provocado el haber sufrido tal circunstancia pero en el caso de las víctimas de violencia de género las dificultades y la situación de vulnerabilidad se acrecientan a través de la dirección de justicia el departamento de trabajo y justicia gestionamos el servicio de atención a la víctima esta figura administrativa adoptada

para su desarrollo es la de contrato derivado del correspondiente concurso público

víctimas de violencia es una herramienta que pretende aliviar el impacto emocional del procedimiento judicial permitiendo a la mujer afrontar estas experiencias como citaciones

la necesidad del acompañamiento se deduce además del desconocimiento del entorno y del lenguaje jurídico y judicial

que puede ser de vital importancia para ella a esto habría que añadirle la posible participación de los hijos e hijas que también serán acompañados por las personas que prestan el servicio otra circunstancia que evitar es el posible encuentro con el victimario en el palacio judicial o en las inmediaciones

localización ubicación de las distintas dependencias judiciales y la contención emocional en caso de ser necesaria no obstante las circunstancias de las víctimas no son todas iguales por ello corresponderá al servicio de atención los equipos psicosociales judiciales

o los diferentes juzgados valorar y determinar el tipo y nivel de acompañamiento requerido este nuevo servicio se ubica en el palacio de justicia de bilbao

y cuenta con la asistencia técnica de cinco personas especialistas en el campo social y

el proyecto piloto se puso en marcha el pasado uno de octubre y se desarrollará hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte el coste del servicio se acerca a los doscientos cincuenta mil euros

que el acompañamiento integral tiene en las víctimas de violencia de género y poder tomar las decisiones oportunas para ampliarlo y corregir

en aras a mejorar la atención a las víctimas es una obligación que contraemos como ejecutivo

a aliviar los efectos destructivos que la violencia de género tiene y procurar entre todos y todas la desaparición de esta lacra social besterik ez eskerrik asko

señor lehendakari llueve y hace frío se acerca el invierno

en los datos económicos y en los datos de empleo yo le pregunto hoy por los últimos que hemos venido conociendo singularmente por los datos que conocimos del tercer trimestre son malos

sin duda un cambio de tendencias en un contexto que es complejo en un contexto que es preocupante cayó la población ocupada cayó la población activa también aumentó el paro

como le digo el contexto no favorece y parece que la situación es difícil no le voy a glosar los datos porque yo le pregunto por la valoración que usted hace de ellos y cuál es la situación y qué podemos esperar para

en nuestra comunidad pero le he escuchado en la pregunta de cortejo que le ha hecho el otrora azote de la casta señor lander martínez decir

este gobierno que se quiere formar si sale pues pueda liquidar la reforma laboral que

de crisis en la que vivíamos favoreció que con crecimientos del dos por ciento pudiéramos estar en fase expansiva también del empleo en españa y yo creo que

con el gobierno que se puede formar que parece que se quiere formar entre el partido socialista y unidas podemos y creo que eso introduce un factor más de complejidad y me parece que puede complicar el futuro

me despeje la preocupación que yo tengo con las políticas económicas que se anuncian eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

me pregunta por cómo valoro los últimos datos de desempleo del país vasco y yo los valoro como siempre con perspectiva como un indicador más de una tendencia general

nos muestran dos realidades es cierto que en octubre ha habido mil setecientos personas más inscritas en lanbide en demanda de empleo

tan cierta es una cosa como la otra esto significa que la población activa a la que usted ha hecho referencia señor alonso la población activa se ha incrementado en diecisiete mil setecientos personas la gran mayoría ha encontrado empleo

es positivo en todo caso crear más y mejor empleo es y va a seguir siendo nuestra prioridad tenemos mucho por hacer y le garantizo que todo el gobierno está centrado

de cara a lo que es la situación socio económica crear más y mejor empleo es lo que tenemos fijado como prioridad en nuestro programa dentro del programa marco de reactivación económica

los datos yo le digo los que toman en eurostat es la epa del tercer trimestre la disminución de la población activa del tercer trimestre del cero coma noventa y dos por ciento en el país vasco en el conjunto de españa esa

y la tendencia es preocupante pero yo le he visto ilusionado como digo con este nuevo gobierno cuyo programa no conocemos nadie

si ustedes quieren parece que ustedes quieren y les veo con gran entusiasmo incluso se anuncia

lo cual no parece halagüeño para las expectativas de empleo o no es lo que nosotros pensábamos antes también hemos escuchado a parte de la reforma laboral que hay una voluntad de incremento del gasto público una voluntad de incrementar también los impuestos

y además ustedes están de acuerdo con lo que le estoy diciendo y usted lo sabe y puede

y estas cosas que pasan en madrid pues a usted los de podemos ahora le vayan a aprobar el presupuesto

para terminar su legislatura y yo creo que tiene usted que tener cuidado con una cosa

y que los datos de empleo con medidas que son temerarias

disolverlo por falta de presupuestos sino para que no le caigan en la cabeza los malos datos económicos y de empleo en el país vasco el próximo año y usted me dirá usted es un agorero es que ya hemos visto esta película antes

y ahora parece que ustedes tienen confianza en pedro sánchez y yo entonces ya he llegado al límite de mi asombro porque va a resultar que los del pnv son los únicos

en la agenda vasca el empleo de los vascos también eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

sabe por lo tanto lo que voy a hacer sabe todo lo que en principio entonces si lo sabe no sé para qué me pregunta entonces

de acuerdo muy bien quedará constancia en el diario de sesiones señor alonso es por si acaso yo no sé lo que pienso o no sé lo que creo que va a suceder en todo caso señor alonso le reitero que nuestro reto de país es reducir el paro por debajo del diez por ciento para dos mil veinte en este momento es de nueve coma dos por ciento y hemos alcanzado las novecientos setenta y ocho mil personas cotizantes a solo cuatro mil del máximo histórico de dos mil ocho no es suficiente

tenemos que lograr la creación de empleo en las veintiuno ramas de actividad económica

dieciséis ya crean empleo hace cinco años señor alonso había setenta y ocho personas en paro por cada vacante hoy se han reducido a veinte tenemos que generar más oportunidades y contribuir a mejorar la calidad del empleo apoyar especialmente a las mujeres la juventud y las personas paradas de larga duración

que vaya a existir gobierno español pueda hacer estamos avanzando con el programa marco de reactivación económica y empleo y vamos a cumplir los objetivos fijados al inicio de esta legislatura autonómica más de cuarenta y cinco mil empleos incentivados

contamos con activos importantes objetivos de deuda por cierto señor alonso

la reforma exprés de la constitución apoyando al partido socialista obrero español en lo que es la imposición del objetivo del déficit y nosotros cumplimos con el objetivo de déficit

la innovación la internacionalización y la industria la situación

seguir apoyando a la empresa y la economía productiva para superar las dificultades beraz alonso jauna enplegu gehiago eta hobea sustatzea da gure lehentasuna

zer esan nahi duen bederatzigarren puntu horrek mucho tuvo que pedalear el señor

dar una respuesta medianamente serena de lo que plantean en ese artículo noveno orduan guretzat egoera

lo que somos gracias a una trayectoria histórica de trabajo constructivo de las generaciones que nos precedieron

a lo que es intolerante e intolerable lo construido en euskadi en materia de convivencia es una activo colectivo conquistamos una convivencia libre del totalitarismo de la dictadura franquista hemos conquistado una convivencia libre del terrorismo de eta y la violencia

y con memoria crítica del pasado hemos construido una convivencia asentada en la cohesión y la justicia social con la aspiración compartida de alcanzar la máxima igualdad posible ante los movimientos populistas y demagógicos lo importante es seguir invirtiendo en cohesión y justicia social y esta tiene que seguir siendo nuestra prioridad esta es por tanto la primera propuesta valorar y reforzar el suelo que nos sostiene convivencia y cohesión social es nuestra primera fortaleza frente a cualquier neototalitarismo

hirugarren proposamena aniztasuna aktibo gisa aitortzea da la pluralidad es una activo positivo

neototalitarismos significa mantener viva la fuerza de unas voluntades sociales plurales e inmensamente mayoritarias que defienden el plurales social a pesar de cualquier diferencia

nos debemos mantener unidos en la defensa de los derechos humanos el pluralismo y las libertades fundamentales esto nos exige una mayor responsabilidad

prepolítico de la cohesión de nuestra sociedad en torno a las bases democráticas fundamentales ezer ez da beraz egintzat edo behin betiko irabazitzat jo behar

debemos mantener una unidad social y política que haga efectivo

ultra de obtener ventaja política o electoral mediante la utilización de mensajes populistas debemos evitar actitudes que permitan

haciéndole partícipe de acuerdos institucionales o dando viabilidad a sus propuestas

lo que en europa se denomina alfombra roja a la extrema derecha ha dado lugar a una factura muy cara en las pasadas elecciones en europa en el estado y en euskadi se pueden defender todas las ideas en democracia y sin recurso a la violencia de hecho vox pretende ilegalizar a quien defiende ideas fuera de la constitución pero en realidad

están defendiendo algo que también está fuera de la constitución como es la ilegalización de un partido político

o más si cabe la supresión de las autonomías en democracia todas la ideas pueden ser defendidas libre y pacíficamente esta es la esencia

esan duzu que en democracia todas las ideas deberían de ser deberían de ser

de los neototalitarismos en el estado en plural en europa o en el mundo

imprescindible trabajar una pedagogía democrática para la comprensión la valoración la defensa y la promoción de los valores democráticos los derechos y libertades fundamentales y todo ello sobre la base o del equilibrio la cohesión social

que considero básicas a trabajar también en este ámbito parlamentario primera valorar y reforzar lo construido el suelo que nos sostiene

tercera cuidar el acuerdo plural de las voluntades sociales mayoritarias entorno a los derechos fundamentales cuarta compromiso con europa como espacio de unidad que debe ser promovido y defendido y que debe promover

una unidad social y política también europea que haga efectivo el peso de su mayoría democrática

en el rechazo social a la intolerancia y en la férrea defensa de los derechos humanos son para mí las dos caras de la misma moneda democrática
y en ello me voy a empeñar eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

que por fin las violencias machistas sean centrales en este parlamento

que el propio gobierno incluso se pregunte por estos temas y lo que más me alegra

y lo que nos alegra a elkarrekin podemos es saber que nosotras hemos sido motor y parte de este cambio

las mujeres y desde elkarrekin podemos volvemos a renovar y redoblar nuestro compromiso firme con los derechos
y libertades de todas las mujeres las niñas adolescentes jóvenes y adultas isiltasuna mesedez

estamos convencidas de que el camino por avanzar hacia una sociedad más justa más igualitaria por construir y defender una

que afrontemos con medidas y políticas diversas las violencias machistas prevención atención protección

de no repetición son todas imprescindibles para una política integral en la materia

más énfasis en unas que en otras y hasta el momento se ha dejado de alguna manera relegada

las violencias machistas son una vulneración de derechos humanos sistemática y estructural es decir organizada y establecida dentro de la estructura social machista

en lo que se llama relaciones privadas su explicación tiene que ver con la sociedad se trata de la violencia contra las mujeres esas que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo todos los días y en todos los ámbitos de su vida este tipo de violencia no se limita a una cultura religión o nivel socioeconómico en particular ni a grupos específicos de mujeres dentro de una sociedad aunque la situación de unas y otras mujeres sea bien diferente les une

subordinación con respecto a los hombres que adquiere muy distintas manifestaciones

contra la convivencia y que tiene consecuencias muy graves para las mujeres para sus familias y para toda la sociedad en euskadi a lo largo del año dos mil dieciocho la ertzaintza registro dos mil novecientos ochenta y nueve mujeres agredidas por su pareja o expareja otras ochocientos setenta mujeres

y trescientos ochenta y cinco mujeres que sufrieron violencia sexual fuera del ámbito familiar en total cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro mujeres

en el periodo de un año en dos mil diecisiete

y el número de denuncias aumenta porque las mujeres continúan conquistando derechos y libertades están perdiendo el miedo a denunciar las violencias

lesbianas racializadas trabajadoras domésticas autónomas o empleadas precarizadas pensionistas estudiantes

sus voces y reivindicaciones están dando saltos cualitativos avanzan y desbordan las formas tradicionales están abriendo caminos hacia una sociedad más justa

la sociedad en su conjunto es cada vez más sensible y está más concienciada cada vez son más las mujeres que dan el paso para denunciar sin embargo contamos con unos datos que nos da una fotografía de la situación de aquellas mujeres que pueden y eligen denunciar en comisarías o juzgados

se estima que en torno al cuarenta y ocho por ciento de las mujeres que sufren violencia en el ámbito de hogar no han acudido a la policía al juzgado ni a ningún servicio de ayuda nunca

aumentando en lo que vamos de año en dos mil diecinueve tenemos cien denuncias más con respecto al mismo periodo

con estos datos en la mano que insisto no reflejan la totalidad de la realidad cada día más de quince

en definitiva se trata claramente de una constante y sistemática vulneración de los derechos humanos de la mitad de la población y tratándose de una

humanos consideramos que es imprescindible y necesario hablar de memoria de reconocimiento y reparación porque las políticas en el ámbito de la memoria colectiva histórica en el ámbito del reconocimiento y reparación sitúan las vulneraciones de derechos humanos como una cuestión política y estructural

se han realizado grandes avances sí para el reconocimiento de las violencias machistas como una vulneración de derechos pero sin embargo no se ha conseguido hasta ahora

hay todavía un gran campo de trabajo por explorar y avanzar en políticas de memoria de reconocimiento y de reparación en este ámbito la reparación

machista debe formar parte de la atención integral y son una herramienta bajo nuestro punto de vista fundamental

por todo ello señor lehendakari le lanzo esta pregunta cuáles son las políticas en el ámbito de la memoria reconocimiento y reparación que el gobierno vasco tiene previstas

señora arana yo no soy ni adanista ni creo que tampoco evista no creo que conmigo

en todo caso cuáles son las políticas en el ámbito de la memoria reconocimiento y reparación que el gobierno vasco tiene previstas para las víctimas de violencias machistas

el gobierno vasco ha reafirmado el compromiso de plantear actuaciones en todos los planos de la intervención prevención detección atención protección coordinación y justicia haciendo hincapié en la importancia de la reparación a las personas víctimas

en el caso de las víctimas de la violencia machista se entiende que el fin es la mejora sustancial de las condiciones de vida de las víctimas a partir de la reparación de sus derechos

asimismo se ha de apoyar el proceso de empoderamiento que refuerce su capacidad y autonomía para superar la situación de violencia desde el gobierno vasco

estamos impulsado el principio de reparación a través de distintas acciones e instrumentos en este sentido el séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres ha incorporado la primera vez

en concreto se recoge el objetivo estratégico de garantizar el derecho a la reparación individual del daño para que las mujeres puedan culminar su proceso de salida de la violencia

el derecho a la reparación colectiva evitando la revictimización se entiende como una forma de mostrar el compromiso institucional contra la violencia contra las mujeres

incrementar los recursos públicos de forma que se contribuya a la completa y total recuperación

afirmando y reconociendo su diversidad y la de los impactos de la violencia en cada una de ellas de la misma forma queda recogido el objetivo

a la violencia contra las mujeres el respeto a las supervivientes dándoles voz a ellas para asegurar la difusión de la verdad y el reconocimiento social de lo vivido en esta misma línea se plantea explorar fórmulas para garantizar la no repetición del daño poniendo la atención en quien lo causa de forma que se asegure a todas las mujeres

y por último el plan recoge el objetivo de reconocer el derecho a la indemnización económica proporcionada

los objetivos planteados en el plan de igualdad tienen su traslación a los compromisos asumidos por el gobierno vasco y el conjunto de las instituciones públicas

y que ha puesto en marcha la red de municipios vascos por la igualdad

actuaciones locales para la reparación de las víctimas de violencia machista esta guía ofrece o favorece que las entidades locales puedan llevar a la práctica y concretar el derecho de reparación de las víctimas

la guía propone también dotar de más recursos técnicos a los ayuntamientos y mancomunidades en la tarea de mejorar la situación de las víctimas aplicando el principio de reparación

escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas esta guía abre un nuevo camino y su objetivo general es conseguir que los municipios vascos puedan conocer debatir e implementar el principio de la reparación a las víctimas de la violencia machista

de actuación a la atención de las víctimas de todas las formas de la violencia machista en todos los ámbitos en los que se manifieste además de la

importante destacar también la coordinación con las diputaciones forales de cara a la prestación de atención especializada un principio básico en todo proceso de recuperación de las víctimas es el apoyo psicológico durante todo el proceso comenzando desde el momento mismo de la detección para dar respuesta a este principio el decreto ciento ochenta y cinco barra dos mil quince que regula

la atención especializada a las víctimas ante situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres así los servicios sociales de atención psicológica

un tratamiento psicológico mediante una atención individualizada y personalizada los servicios psicológicos abordan las necesidades psico emocionales

independientemente del ámbito en el que esta se haya producido y estos servicios también atienden a los hijos e hijas de las mujeres este servicio ofreció su atención y apoyo

el pasado año el reconocimiento de los derechos económicos y la indemnización a las víctimas es también una realidad

recoge el objetivo de reconocer el derecho a la indemnización económica proporcionada en la que se consideren todos los impactos de la violencia sobre las supervivientes

suficientes en los casos en los que una persona víctima de violencia de género solicita la renta de garantía de ingresos lanbide pone a su disposición personal especializado

lanbide atendió el pasado año a ochocientos cincuenta mujeres víctimas destinando a este fin una inversión de seis millónes y medio de euros de forma complementaria

de violencia de género esta es una ayuda económica que se abona en un solo pago y está dirigida a mujeres víctimas de violencia de género que tengan especial dificultad

con doscientos treinta hijas e hijos a su cargo recibieron esta prestación económica que supuso una inversión superior al millón de euros por parte del gobierno vasco

gakoa orientado a la atención psicológica y reeducación de los maltratadores por orden judicial trabajamos también

en la formación de profesionales que atienden a las mujeres que enfrentan violencia con el fin de que su intervención ponga en el centro el empoderamiento de las mujeres esta relación que le he citado señora arana es parte del

que desarrolla el gobierno y el conjunto de las instituciones vascas no solamente el gobierno vasco para dar respuesta al reconocimiento y reparación que merecen las víctimas de violencias machistas y vamos a seguir comprometidos con la igualdad la próxima semana el gobierno vasco va a participar en el women leaders global forum de reikiavik donde presentaremos también el modelo

y además adelantaremos el compromiso de que el quince por ciento de nuestro presupuesto en dos mil veintiuno contemple

eskerrik asko lehendakari jauna mire este miércoles pasado mujeres de este parlamento estuvimos en la upv de donostia en una mesa organizada por el consejo de juventud de euskadi para hablar de política de cómo nos atraviesa a cada una como mujer mujer y política un gran debate que se debería organizar más y que vendría muy bien que muchos hombres fueran de oyentes no lo digo en plan mal lo digo de verdad porque dijimos ahí cosas muy importantes y estábamos muy de acuerdo en muchísimas cosas pero yo en esa mesa dije que yo no me conformo

y creo que es un momento de ser valientes creativos escuchar ejecutar tender puentes y construir juntas

por nuestra parte vamos a seguir investigando escuchando al movimiento feminista analizando las políticas que este gobierno está poniendo en marcha y a decir que no nos vamos a conformar con lo que hay

intervención repito sí se han realizado avances indiscutibles en el reconocimiento de las

muy importante pero porque hace tan solo cuarenta años estaban naturalizadas se consideraba mucho una problemática familiar y que se debía de resolver en ese ámbito no había legislación no se reconocían

sujeto político pero hay que redoblar esfuerzos debemos continuar consolidando los logros y también debemos continuar avanzando con nuevas medidas y políticas en ese cambio porque ante los avances indiscutibles en diferentes lugares de europa y aquí cerca

emergiendo contrarios a la igualdad a los derechos y a la libertad de las mujeres

y creemos que las políticas de memoria y reconocimiento es una herramienta fundamental para divulgar la verdad y una cultura que blinde los derechos humanos de las mujeres y construir una sociedad

a la violencia contra las mujeres el respeto a las supervivientes dándoles voz a ellas para asegurar la difusión de la verdad y el reconocimiento evitando la revictimización y hace un par de años en un debate organizado por pikara y feministalde en torno a esta cuestión se decía

da impunidad social a los agresores y no permite reconstruir los relatos de vida ni la propia memoria o de las hijas e hijos de las mujeres que han sufrido violencia

y efectivamente es bastante seguro que a cualquiera de las personas que estamos aquí pues nos costará nombrar a cada una de las mujeres que fueron asesinadas

y ese es el resultado en gran medida de la falta de unas políticas sobre memoria y reconocimiento en algunos municipios como usted bien ha comentado

pero tenemos que reconocer que son acciones más bien puntuales fragmentadas de corto alcance y sin articulación entre sí hay muchísimo margen de mejora hasta que podamos

y supervivientes de violencias machistas y voy a poner solo algunos ejemplos que creemos que pueden ser buenas para impulsar la memoria por ejemplo meta fundamental de las políticas de la memoria es luchar contra el olvido para ello es preciso investigar conservar objetos y documentos en archivos y garantizar

mediante una política de difusión adecuada otro ejemplo es impulsar actos de reconocimiento y conmemoraciones públicas con reparación

la educación es otro ámbito fundamental para la transmisión de la memoria y en este sentido también hay un amplio margen para impulsar nuevas actuaciones en las que las víctimas y supervivientes de violencias machistas puedan brindar sus testimonios es una actividad con un gran potencial educativo también es importante

y se materialice con objetos concretos como pueden ser unos monumentos los nombres de las calles etcétera

pero sobre todo hay que subrayar que están orientadas fundamentalmente al futuro ser un puente entre pasado presente y futuro recordar para no repetir son un llamamiento a construir un futuro

integrales sobre memoria reconocimiento y reparación de las víctimas de violencias machistas besterik ez eskerrik asko

y estoy de acuerdo en que no hemos de conformarnos y por lo tanto que hemos de seguir trabajando para avanzar todavía mucho más de forma paralela a la

usted ha hecho mención también a la memoria a la reparación o a la memoria reconocimiento y reparación sobre lo que ha puesto también determinados ejemplos es necesario también seguir profundizando en la labor de sensibilización social a la que usted también ha hecho

recoge el objetivo de incrementar el número de acciones públicas en las que

el rechazo a la violencia contra las mujeres y el respeto a las supervivientes y se plantea dar voz a las propias víctimas para asegurar la difusión de la verdad y fomentar el reconocimiento social de lo vivido evitando la revictimización

y en relación también con los testimonios que usted hacía mención es el desarrollado por emakunde para realizar la película volar como usted bien conoce

en este proyecto nueve mujeres con un pasado de violencia de género relatan en primera persona sus experiencias y recorrido vital la película surge a iniciativa de las mujeres protagonistas y es el fruto de su comprometido y valiente trabajo contra la violencia de género y a favor de la reparación de las víctimas

promocionó la creación de esta película con el objetivo de que sus testimonios

en motores de cambio se trata de comprender en profundidad cómo afectan estos hechos a las propias mujeres y su entorno y qué consecuencias se derivan de los mismos

y está siendo difundida también fuera de euskadi muestra

y se convierte además en un reconocimiento a quienes han sobrevivido a la violencia y a quienes se están enfrentando a la misma sin ser debidamente comprendidas

referencia a que la memoria reconocimiento y reparación de las víctimas de violencias machistas está recogida también en la modificación de la ley para la igualdad

así la memoria afirma la necesidad de reconocer y garantizar el derecho a la reparación de las víctimas en línea de lo que dicta el convenio de estambul la ley reconoce el derecho de las víctimas a la reparación y plantea la obligación de adoptar medidas para garantizar a las víctimas y supervivientes

el reconocimiento de la verdad la garantía de no repetición de los hechos violentos y una completa recuperación a través de los correspondientes recursos públicos de atención el compromiso del gobierno vasco señora arana es que una vez aprobada la ley se desarrollará reglamentariamente la forma en que dará cumplimiento a este mandato

de que la nueva propuesta normativa nos va a brindar una oportunidad para seguir profundizando y dando respuesta adecuada a este enorme desafío social que tenemos

lehendakari consejeros consejeras señorías con una exposición de motivos de catorce párrafos con catorce artículos con seis disposiciones

el gobierno vasco envió al parlamento en verano el proyecto de ley de lugares y centros de culto y diversidad religiosa

aún está pendiente su tramitación parlamentaria pero tenemos algunas dudas sobre su contenido normativo por eso mismo nosotros hemos hecho esta pregunta al lehendakari

este proyecto de ley forma parte de su responsabilidad y solicitamos al lehendakari que dé respuesta a una pregunta en relación con el proyecto de ley de ese departamento suyo

que aporta el proyecto de ley de centros y lugares de culto y diversidad religiosa en la comunidad autónoma vasca a nuestro ordenamiento jurídico es decir qué aporta

y qué aporta la ley en cuanto al consejo interreligioso de euskadi que crea muchas gracias eskerrik asko

señor barrio la sociedad vasca como otras sociedades europeas desarrolladas presenta hoy un panorama de creciente pluralidad religiosa el objetivo del proyecto de ley es proteger la convivencia la diversidad y el derecho a la libertad religiosa en nuestra sociedad

en la posibilidad de contar con espacios y centros de culto normalizados que respondan a la diversidad religiosa el valor normativo por el que usted me pregunta el valor normativo de este proyecto de ley se fundamenta en cuatro garantías

y confesiones religiosas unas condiciones óptimas de seguridad y salubridad en la apertura y utilización de lugares y centros de culto

y de culto en condiciones de igualdad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

no regula nada tal y como se ha presentado todo lo que usted nos ha dicho ya está regulado por otras normativas

podemos discrepar o no de cómo se regula algo tener una idea de cómo se normativiza alguna cuestión compartirla o no compartirla

de ley lehendakari no regula nada o todo está regulado por otras normas o lo tiene que nombrar usted a posteriori vía reglamentaria

la apertura y funcionamiento de los centros y lugares de culto y la otra la creación del consejo la primera depende de todo un conjunto de normativa municipal urbanística protección de medioambiente y ley de orgánica de libertad religiosa que ya están en funcionamiento que ya

en la práctica diaria en relación con la apertura en relación con el funcionamiento de los centros de culto y lógicamente de todos los centros de culto es decir y los ayuntamientos y la normativa municipal ya nos ha demostrado cómo se pueden llevar a cabo todas esas aperturas y todo ese funcionamiento todo ese control de salubridad con normalidad es decir el control de salubridad que usted pretende también

esta ley lo que hace es rebajar del carácter legal a fundamentalmente ser reglamentario y por otro lado es decir en lo segundo

lo único que decide verdaderamente esta ley es que usted

la composición la ley lo dice la composición funciones y normas de funcionamiento del consejo interreligioso de euskadi deben ser aprobadas por reglamento

permítame el consejero de ese departamento ya que depende de usted es decir este proyecto de ley crea pero no regula en consejero interreligioso vasco y eso es lo que tendría que hacer usted eso a nosotros no nos parece bien

de centros y lugares de culto y diversidad religiosa de la comunidad autónoma vasca no es en sí mismo un proyecto normativo es pose es una estética es un número más en la lista de proyectos de ley es un anuncio de que usted va a nombrar un consejo interreligioso de euskadi y de que los ayuntamientos van a seguir haciendo lo que ya

le interesa a usted de verdad este proyecto de ley muchas gracias eskerrik asko barrio jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor barrio a quien parece que no le interesa es a usted en todo caso le insisto el proyecto de ley

de discriminación entre diferentes confesiones religiosas y además establece también con carácter normativo sí la creación del consejo interreligioso vasco como marco de diálogo para la convivencia y el consejo

en las iniciativas y decisiones de las instituciones vascas todos los ordenamientos jurídicos democráticos así como la normativa internacional de los derechos humanos

como un derecho fundamental dotado de las máximas garantías jurídicas

constituye un refuerzo normativo de las garantías en el ejercicio de ese derecho fundamental el proyecto de ley ofrece una respuesta normativa coherente viable y plenamente conforme con los principios del ordenamiento vigente a una realidad social emergente y el proyecto de ley determina los planes municipales de ordenación urbanística que existan o los que puedan existir contemplen reservas para equipamientos de carácter religioso

comunicación de apertura y otras autorizaciones de actividad condiciones técnicas y materiales de obligado cumplimiento así como medidas contra el incumplimiento de las condiciones de apertura

para fines religiosos y contempla la posibilidad de que los ayuntamientos destinen lugares locales o edificios de uso público a fines pluriconfesionales señor barrio sabe usted que este proyecto de ley esta iniciativa viene ya de la legislatura anterior

de tramitación parlamentaria de este proyecto de ley tiene usted por lo tanto ocasión en la medida en que tenga interés en este proyecto de ley en que exista

disposición adicional quinta herramienta financiera de apoyo a las instituciones locales eta

en su aplicación constituirá una herramienta financiera para el apoyo a las entidades locales

el objeto de esta herramienta será facilitar las inversiones derivadas de esta ley en el ámbito de la administración local

por medio del retorno de las ayudas recibidas por parte de las administraciones que reciban financiación previamente en función de los retornos derivados del ahorro energético

hori qué más en los últimos años desde luego estamos desarrollando una dinámica importante en cuanto a cumplir esa ley que también tiene

otra serie de elementos que hay que poner en funcionamiento como es la de subvenciones y la de implementar políticas que permitan que el conjunto de la sociedad

nos pongamos en funcionamiento y utilicemos cada vez más dos elementos importantes por una parte la de conseguir que la energía que consumamos y generemos si es posible sea verde

de la eficiencia energética en sí misma y del menor consumo energético

y lo dice la ley divulgar por parte de las administraciones públicas vascas información sobre sostenibilidad energética planes de formación y actuación

qué más un desarrollo normativo posterior a la ley por una parte un decreto que tiene que

y la puesta en marcha de un plan territorial sectorial de energías renovables al que usted hacía referencia

ya está en este momento en marcha en la redacción del plan territorial sectorial que no hace solo referencia al eólico

en redacción por tanto vamos a ampliar el ámbito más allá de lo que era el pts previo que era un pts puramente eólico y además

y uso de los datos energéticos de facturación por parte de los usuarios que permitan

diferentes políticas particulares que pueden poner en marcha los usuarios privados eso también lo dice la ley en cuanto

el pasado lunes aunque fue bastante rápida la presentación bueno nos vamos a centrar desde el ente vasco en la energía en ayudas

eficiente en un plan renove de vehículos que creo que es lo único que recogían los medios de comunicación pero continuaremos con ese plan renove y el programa moves que incentiva especialmente la movilidad eficiente considerada como

todos los puntos de recarga necesarios para su desarrollo asimismo hay ayudas de eficiencia energética y solar térmica para todo el sector terciario y para el sector industrial así como para administraciones públicas locales luego también hay una parte de

diferentes elementos en biomasa energía geotérmica todo tipo de energías renovables por supuesto eólicas y fotovoltaicas energías marinas

diferentes tipos de actuaciones en demostración y validación de nuevos elementos industriales y continuamos con las ayudas a eficiencia energética sobre todo encaminadas a pymes pero al conjunto del tejido industrial porque hemos

y por último también tenemos la herramienta financiera a la que usted hacía referencia una herramienta financiera que el pasado lunes comentaba tiene su dificultad puesto que el nivel de endeudamiento que se pueden permitir los municipios y sobre todo los municipios pequeños tiene unas limitaciones muy no obstante estamos trabajando para qué esos cien millónes a los que hacíamos referencia que no son en un ejercicio sino que son en varios ejercicios puesto que también lo decía el lunes la implementación de estas políticas no se va a llevar a cabo único sino que va a ser un elemento que se va a desarrollar en el tiempo una herramienta financiera que va a estar dotada al menos en estos momentos en ello estamos trabajando con un mix de gestión con una parte que sea subvencional y una parte que nos permita trabajar con una fórmula de financiación como usted decía

con unos años de carencia que nos permita ir abonando el prestamo que se ha dado con los propios recursos conseguidos como consecuencia de los ahorros por la eficiencia energética que se ha puesto en funcionamiento dónde están los recursos se lo decía el otro día los recursos están en el instituto vasco de finanzas e incluso hay una parte subvencional y se podría utilizar incluso de otra manera que estaba en el ente vasco de la energía y recordará usted perfectamente que hacía referencia

aparecían como eficiencia energética en todo caso

con eudel para analizar si realmente esa es la herramienta necesaria si responde a todos sus objetivos y si es así desde luego está funcionando para el primer trimestre del próximo año

veinte y desde luego como corresponde a este departamento las labores de vigilancia de inspección de control del cumplimiento de las obligaciones de la ley también

preocupa por tanto estamos desarrollando todos y cada uno de los elementos contemplados en la ley eskerrik asko eskerrik asko tapia

se constituirá con una cantidad mínima de cien millónes

con una cantidad mínima de cien millónes se está hablando del momento de la constitución de la herramienta y usted me está hablando ya de que los cien millónes serán para varios ejercicios por lo tanto primera cuestión que no acabo de ver

soy consciente de cuál es la limitación de los ayuntamientos en relación a su capacidad de endeudamiento que eso es otro tema que da para mucho y es mi tema pero para otro día como diría aquel pero la realidad es que son palabras y son palabras que vienen a raíz

es decir estas cuestiones usted sabe perfectamente que fueron pactadas en una negociación de una ley eh bildu y el resto de grupos y evidentemente el gobierno estaba presente y no creo yo que hubiera pasado nada si ustedes hubieran levantado el teléfono y hubieran llamado al señor otero

de que para hacer eso que habían pactado y que el señor otero les dijo expresamente que tenía vital importancia encontrando con dificultades legales financieras o lo que estime oportuno no creo yo que hubiera pasada nada por eso le decía yo en mi primera intervención hay un problema en su modelo de gobernanza o hay un problema con las confianzas que se van trabajando porque una y otra vez se nos dice que hay que trabajar confianzas yo creo

de buena tinta que se trabajaron esas confianzas pero lo mínimo hubiera sido pues que después de haber hecho y usted lo sabe intentos por saber qué pasaba con esta historia

de las primeras informaciones y veo que se las van pasando en directo en vivo y en directo

señora tapia yo no le voy a poner en duda los diecisiete millónes que me dice aparentemente cómo no le gustó lo que salió del lunes de su comisión porque solo hablaron del plan renove pues hoy ha utilizado usted esos millónes

pero también eso es una de las cuestiones que podemos ver a posteriori que ustedes vendan las bondades de su departamento dentro de unos meses

un dinero para ayuntamientos para hacer cuestiones relacionadas con las energías renovables y que no sea una cuestión que está hoy

no es solo que no estén los cien millónes como partida nominativa que ponga

yo evidentemente en los presupuestos del instituto vasco de finanzas los he observado

que podría ser donde usted localiza esta cuestión pero evidentemente no llega a los cien millónes ni por asomo pero la cuestión es que en la letra tampoco está es que en la memoria

todas las cuestiones que se van a llevar a cabo en el ejercicio de ayuda a las pyme de avales a empresas no se menciona en ningún momento una línea de trabajo aunque sea a futuro

en la memoria mínimo en la memoria del instituto de finanzas tendría que aparecer por lo menos debería de haber aparecido en el instituto de finanzas más allá

he leído y puede haber una frase que incluso uno leyendo entre líneas puede entender que algo hay pero no hay nada concretado señora consejera

hay mucho que hablar usted sabe perfectamente que aquello también fue una cuestión introducida por el señor otero en aquella negociación

congreso de iberdrola que había un acuerdo sobre eólicas entre su gobierno

y ya el culebrón posterior como solo me quedan diez segundos

no lo voy a relatar pero insisto en este presupuesto tenía que haber habido algo señora

eskerrik asko mahaiburu anderea señora tapia en enero de dos mil diecinueve el gobierno vasco acordó junto con la federación vasca del taxi y representantes de las vtc de euskadi que trabajarían para avanzar

una nueva normativa vasca que regulara el sector de las vtc el pasado treinta de octubre como usted ya sabe

y empezaba a operar en bizkaia con una veintena de vehículos ante esta situación qué va a adoptar el gobierno vasco para regular la actividad de las vtc en euskadi y

frente a un modelo de transporte privado que deteriora las condiciones laborales eskerrik asko

señora garcía tal como usted decía fue el pasado dieciocho de diciembre cuando constituimos la mesa conjunta entre

estaban presentes la federación vasca del taxi que integra el noventa por ciento de los taxis de euskadi y las vtc vascas las diferentes asociaciones que existen

adecuar la normativa vigente regular las dos actividades porque son realmente diferentes y hacerlo de una forma acordada de una forma consensuada con los dos sectores

y considerando que era mucho más eficaz hacerlo así durante prácticamente un año con dos elementos que creo que son diferenciales respecto a otras comunidades autónomas y es que somos los únicos

y en segundo lugar tratando de regular y de desarrollar un decreto propio una normativa propia que nos lleve precisamente a definir muy bien que queremos hacer y siempre

el objetivo del decreto por tanto es definir exactamente cómo tienen que trabajar los taxis cómo tienen que trabajar las licencias de vtc cómo tienen que compartir el espacio siempre con el propósito de ofrecer el mejor servicio al ciudadano lo hemos estado trabajando durante un año y estamos en la última fase de ese decreto estamos pendientes de la elaboración del informe de la cojua y desde luego hemos tenido en exposición pública el decreto durante mucho tiempo

uber también hemos mantenido una reunión con el sector las vtc y los taxis y nuestra voluntad es terminar desde luego el

para que entre en vigor cuanto antes posible siendo conscientes que regula dos actividades distintas que estaban ya previamente recogidas en la lott
que no se cumplían en muchos de los lugares pero que desde luego nosotros queremos cumplir eskerrik asko

como uber y cabify que bajo el paraguas de la economía colaborativa

en euskadi ratificamos nuestra total oposición a este tipo de multinacionales que hacen mal uso de la economía colaborativa para escapar a las normativas laborales

nos disgusta y nos genera preguntas y mucha desconfianza

conocido el rechazo por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios

y tiene que reconocerme señora consejera que han tenido ustedes tiempo de sobra desde

cuando acordaron en la mesa de trabajo que comparten miembros de su departamento con taxistas y representantes de las vtc articular una normativa que regulara el sector para que entre otras medidas

mínimo de treinta minutos para prestar el servicio y se prohibiera la captación de clientes en espacios públicos

la que ha hecho que su departamento sea consciente de que es necesario articular un marco para que todas las licencias se rijan por un decreto que permita una convivencia

estricta y de la vigilancia de su cumplimiento por parte de todas

ya ha relatado para que su publicación se materialice antes de finales de año pero que durante estos meses no ha sido

de movilidad uber en la oferta de transporte público de bilbao motivó una reunión urgente con la mesa sectorial del taxi y con los representantes de la vtc

que comenzaron desde hace más de un año parece que este tema no es una de las prioridades de su departamento a pesar del gran número de personas a las que afecta

a las diversas presiones y a las voces que desde algunos sectores de la sociedad vasca apelan a que la presencia de los vehículos de alquiler

vtc que en euskadi supondrían un avance y una mejora de bienestar para la ciudadanía en euskadi

suponen un modelo de transporte privado fuera del control público que deteriora las condiciones laborales

sino como usted ya bien sabe falsos autónomos nuestro respaldo por lo tanto a las taxistas

no evita en ningún caso que denunciemos las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de uber

también debemos pedir que estas condiciones mejoren porque son condiciones precarias su tarea señora tapia es no dejarse azuzar por los imprevistos regular la actividad de las vtc en euskadi la del sector del taxi y mantener el compromiso

un decreto que llega tarde y no nos tengamos que llevar las manos a la cabeza ante futuras sorpresas y nuevas irrupciones

señora garcía en primer lugar yo creo que tenemos que diferenciar lo que es la actividad

esas licencias por tanto lo que estamos regulando son dos actividades diferentes que se recogen en el decreto lugar señalarle que la tramitación de un decreto de estas características

prácticamente a la de una ley y tiene muchísimos trámites que realizar no es que de repente porque

uber en bilbao hayamos agilizado la tramitación no la tramitación sigue un cauce realmente complejo con trámites de audiencia como usted sabe a muchas instituciones con muchísimos informes jurídicos de emakunde de multitud y el último es el de la cojua

es donde estamos falta el informe de la cojua y una vez tengamos ese informe recogeremos las aportaciones que se realicen y a partir de ahí las introduciremos en el decreto y lo llevaremos al consejo de gobierno por lo tanto vamos paso a paso y si usted tiene

porque una vez conseguido el acuerdo que no ha sido fácil entre dos actividades realmente distintas recogiendo todos los intereses y garantizando sobre todo

una vez tenido ese acuerdo después desarrollarlo lleva un tiempo pero insisto si usted quiere más detalles le puedo decir cuál ha sido la tramitación

egingo dut la operación que se autorizó a cables y alambres a vicinay concretamente separar los activos de tal manera que pudieran garantizar la viabilidad de la empresa es decir por una parte se ubicaban en una empresa dependiente de vicinay cien por ciento lo que eran los inmuebles y por otra parte lo que era la actividad por qué porque permitía que el endeudamiento que se pudiera realizar sobre la empresa para garantizar actividad

realizarse de mejor manera por tanto la operación que se autorizó no solo no fue mala vamos a decir kaltegarria no generó problemas sino que fue todo lo contrario para tratar de mantener una actividad de una forma de trabajo que se estaba produciendo en una situación de dificultades y que

no fue esa como he entendido que usted ha pretendido decir no fue la autorización de esa operación la que desde luego ha conducido a la situación actual en cables y alambres

las garantías que se le pusieron en su momento en dos mil quince usted las conoce igual que yo

un derecho de tanteo y retracto que le quedaba al gobierno vasco durante diez años en caso de que no se cumpliera en diciembre de dos mil dieciocho el acuerdo

para nuestra sorpresa no solo incluyó el poder vender el suelo antes con razones de separar los activos o de cuadrar el balance financiero de la empresa que dice usted eso nos lo respondieron por escrito sino también

nos pareció en su momento un error grave y nos lo sigue pareciendo no se necesitaba para la separación de activos eliminar el derecho de tanteo y retracto porque lo ha sucedido ahora con la empresa es que da la sensación

de que ha sido una especie de coge la pasta y corre o en este caso coge el terreno y corre y esto nos preocupa en dos mil quince ya se sabía que esos terrenos tenían la posibilidad de ser urbanizables

y el hecho de que el gobierno vasco que tenía eso terrenos que era propietario de esos terrenos

que ahora ya no tenga ese derecho de tanteo y retracto significa que la empresa cierra

cierra la actividad industrial y vende esos terrenos como urbanizables perfectamente

esta mala gestión del dinero público señora tapia ya ha sucedido en más casos ha sucedido

en eibar ha sucedido con la naval y nos preocupa porque lo que cables y alambres necesita en caso de que siga que a mí me gustaría que nos dijera qué va a hacer el departamento también para que pueda seguir la actividad industrial de cables y alambres

entonces si el gobierno tenía un terreno industrial y ya no lo tiene y se lo puso en manos

y la empresa ahora lo cierra antes incluso del plazo que se había comprometido y lo vende con qué defensa se quedan los ciento veinte trabajadores y trabajadoras

qué conseguimos qué consigue este país qué consigue este gobierno qué consigue esta sociedad la empresa vicinay también se comprometió a hacer una serie de inversiones en maquinaria no las hizo no invirtió en medidas de seguridad tampoco lo hizo no hizo un solo plan de negoció

que está igual de mal de lo que estaba pero que encima no tiene terrenos y el gobierno vasco que había puesto los terrenos se ha quedado sin ellos eskerrik asko

lo que la empresa ha decidido los planes que ha elaborado su consejo de administración los planes de viabilidad que ha analizado desde luego

de valorarlos nosotros conocemos las dificultades por las cuales están pasando y también conocemos dos cosas más una que la empresa vicinay tiene otra parcela en erandio adquirida por ellos a la que podría haber trasladado esta empresa si esta empresa estuviera en estos momentos en condiciones de viabilidad por tanto

no había en esa empresa en ningún momento voluntad propia de cerrar caesa per se y en segundo lugar lo ha dicho el propio administrador concursal no lo digo yo lo dice el administrador concursal que está en este momento que es responsable de lo que va a ocurrir en esa los recursos obtenidos de todo lo que pueda ser ese concurso incluido el suelo van a ir únicamente a dos lugares uno a abonar las deudas a los trabajadores y trabajadoras y dos a abonar las deudas de los acreedores

que hace de hacer pensar que la empresa se está llevando esos terrenos y ese dinero a su bolsillo y a la empresa vicinay no es cierto lo ha dicho el propio administrador concursal de todas maneras tal como le he dicho antes al señor casanova ha existido voluntad y existe voluntad en vicinay

se han planteado algunas alternativas muy difíciles dada la situación del negocio y del mercado en estos momentos pero desde luego nadie ningún empresario y empresaria de este país y ninguna empresa tiene la voluntad de cerrar

dejar en el desempleo a sus trabajadores sin ninguna razón eso no es cierto y en este caso desde luego el gobierno ha trabajado mucho tiempo le he dicho muchas décadas con esta empresa

vicinay insisto esos terrenos a día de hoy su posible venta va a ser única y exclusivamente para pagar deudas trabajadores y acreedores

muchas gracias señora presidenta señoras consejeras señorías buenos días a todos señora artolazabal me gustaría que hoy

de aspectos de la creación o destrucción de puestos de trabajo en esta comunidad en esta época y para grupos de personas determinados pero yo que he conocido cuál es la voluntad o cómo piensa que se están haciendo las cosas el gobierno pero

y sobre todo que nos cuente un poquito más qué es lo que va a hacer en lo que queda de legislatura esta mañana le han preguntado al lehendakari lo ha hecho el señor alonso

veía el futuro y el lehendakari ha venido a decir que se va a seguir creando empleo y que va a ser empleo de calidad yo no lo comparto

no es precisamente lo que se está creando pero bueno de eso ya hablaremos después usted el

lo primero que dijo habló del tema que realmente más le preocupa a usted me preocupa a mí nos preocupa a todos y es lo que más

a todos los vascos el empleo nos habló del empleo y nos dijo que van a seguir trabajando para conseguir el objetivo de bajar la tasa de desempleo por debajo del diez por ciento y que van a estar muy alertas a los vaivenes internacionales porque estaban dificultando un poco ese ritmo

nuestros vecinos nuestro propio país y nuestros países vecinos y otros que están un poquito más lejos pero que también nos afectan mucho a la vida económica de nuestro país

y yo esperaba que después de decirnos eso nos contara

en el departamento para dar una vuelta a la situación que tenemos de desempleo porque yo pienso y voy a tratar de explicarle por qué

la situación no es buena y usted de hecho la semana anterior nos había dicho que

que veía difícil consolidar la tasa de desempleo por debajo del diez por ciento que ahora mismo estamos en el nueve coma dos como nos dijo usted el martes pasado pero que veía difícil esa situación debido precisamente a cuestiones externas

cuál es su verdadera opinión si la de este martes o la del martes anterior cuando se conocieron esos datos si las cosas van bien y qué es lo que va a hacer de cara al final de la legislatura a usted cuando entró en el gobierno el señor urkullu le llamó le gusta la cocina señora artolazabal

porque nos vamos a entender más fácilmente porque esto del empleo no es tan fácil eso de decir lo vamos a bajar por debajo del diez

nosotros le decíamos todos los grupos de la oposición que era un objetivo muy pobre que ustedes pretendían poco

porque simplemente dejando las cosas como están si manteníamos nuestra estructura económica entre

y esa tasa de desempleo iba a bajar y se iba a quedar por debajo del diez por ciento que creemos los dos que no se va a cumplir a usted el señor urkullu

y usted empezó a hacer la tortilla de patata puso la patata a freír cocerla despacito en aceite batió los huevos puso la sartén al fuego lo encendió echo la sal y empezó a hacer la tortilla de patata y cuando la tortilla de patata ya llevaba dos años de legislatura decidió que era el momento de darle la vuelta a la tortilla le dio la vuelta a la tortilla y

o la situación general apagó el fuego que es lo que nos está ocurriendo que es que

se ha enfriado la tendencia económica y de creación de empleo y de riqueza

desde su partido se ha enfriado por cuestiones internacionales nos da igual cuál es la causa pero lo cierto es que se ha enfriado y a usted se le ha quedado

sin fuego esa tortilla prácticamente sin hacer y va a llegar el final de la legislatura y usted le va a dar al lehendakari la tortilla que le encargó pero todos sabemos que por debajo esa tortilla está sin hacer ese huevo

señora artolazabal usted partía de una base de

personas activas al comienzo de la legislatura en octubre de dos mil diecisiete y novecientos ochenta y siete cuarenta y uno mil personas más

es muy duro decirles a esas ciento quince mil personas que quieren trabajar y que no pueden lo siento

pero aunque llegáramos a ese diez por ciento yo le digo que la tortilla está rota señora artolazabal porque mire en octubre del dos mil diecisiete había dieciocho mil jóvenes desempleados sabe cuántos hay ahora usted sí lo sabe

luego el empleo juvenil que ya estaba en muy mala situación sigue en mala situación había

quiere decir que de los quince mil parados menos que hay en el país

que está afectado los más débiles son los que peor han soportado las políticas

y de los mayores de cuarenta y cinco años otro colectivo muy sensible si teníamos

los más desfavorecidos los colectivos más sensibles son los que peor lo están pasando después de aplicar sus políticas de empleo

de números ahora vamos a hablar de la calidad de ese empleo que se ha creado señora artolazabal hay que probar la tortilla hay que abrirla y hay que esperar a que se enfríe y probarla y cuando usted prueba la tortilla pues se da cuenta de que la tortilla no está muy bien el huevo ha puesto usted que digamos que es las condiciones de empleo de las personas la calidad de desempleo es malo no es un huevo de corral estupendo exquisito de gallina que ha comido exclusivamente grano no no ese huevo no es bueno

el salario medio de los trabajadores vascos no ha crecido como tenía que haber crecido y se sostiene en unos niveles altos ya nos han adelantado otros pero se sostiene en unos niveles altos

son los empleados públicos y eso lo mantenemos con los presupuestos pero las empresas no pueden alcanzar esos niveles porque no les da porque la actividad económica no les da luego los empleados no están bien pagados o no como debieran estar o no como están creciendo en otras partes si había doscientos ochenta y seis mil contratos temporales

octubre del diecisiete hoy hay doscientos noventa y seis mil de doscientos ochenta y cuatro mil en prácticas a doscientos noventa y seis mil usted seguro que se sabe los datos mejor que yo pero lo importante es

han crecido es decir si alguien quiere un trabajo quiere un trabajo bien remunerado y un trabajo

o no como al ritmo que iban creciendo antes y desde luego cada vez hay más trabajos temporales

señora artolazabal ustedes son responsables del empleo público el señor urkullu es el mayor patrón el mayor empleador que tenemos en la comunidad autónoma vasca el mayor patrón de euskadi

iñigo urkullu mantiene la plantilla exactamente igual que cuando llegó esta legislatura

los ámbitos de la administración pública y hoy hay doscientos nueve mil unos cientos arriba unos cientos abajo en tres años no ha creado empleo público el señor urkullu

más alta de toda españa cuando normalmente la gente

lo hace porque está bien remunerada que ya vemos que no mucho

prepara exámenes estudia se forma para pasar esas oposiciones y resulta que aquí tenemos el mayor índice de temporalidad de toda españa ese empleo precario público precario público el que se crea en la parte privada y empleo precario en la parte pública yo por todas estas razones señora artolazabal le digo que la situación no está bien usted me dice que sí con la cabeza y a mí me gustaría que ahora que le va a dar el turno la presidenta
nos explique su opinión gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna denbora bukatu da artolazabal anderea zurea da hitza

señor ruiz de arbulo a mí sí me gusta la cocina y además he hecho muchas tortillas

y creo que además tenían mucho éxito mis clientes

también está cumpliendo con los objetivos que este país tiene y que han de alguna forma depositado su confianza en nosotros para seguir haciendo

creo que además tengo los suficientes recursos de todo tipo para poder llevar adelante y no me estoy quedando sin butano para poder

en lo que me queda de legislatura en lo que nos queda de legislatura este gobierno va a cumplir con el objetivo que el objetivo era

el desempleo por debajo del diez por ciento que yo siempre dije y este gobierno lo ha manifestado que era un objetivo ambicioso y complicado de cumplir

no es nada diferente a lo que inicialmente planteamos en su pregunta usted dibuja y formula un escenario catastrofista en el estado y también como consecuencia en euskadi y atribuye este negro panorama a la salida del pp del gobierno de madrid eso es lo que

y desde luego yo con humildad creo que nada tiene que ver eso con nuestro ámbito en euskadi afirma usted que se ha producido un cambio radical en la situación de los colectivos más vulnerables a la crisis del mercado laboral estamos poniendo iniciativas que están dando resultados a esos colectivos de más vulnerabilidad mujeres parados de larga duración y demás personas con discapacidad en nuestro ámbito administrativo vasco las cosas son muy diferentes a lo que usted está planteando señor arbulo

y con mucho esfuerzo lo estamos consiguiendo entre las empresas la sociedad y las instituciones pero sí que quiero que quede claro que el empleo en euskadi está creciendo

con lo cual estábamos muy cerca de tener los números más elevados de

de toda la historia de euskadi este es el segundo mejor mes de octubre de los últimos diez años el crecimiento de los afiliados a la seguridad social

y estamos solo a cuatro mil setecientos inscritos de conseguir el máximo que logramos en julio del año dos mil ocho

muy pronto superaremos esta cifra histórica llegando al millón de personas cotizantes en euskadi y eso va a ser un buen dato señora arbulo

lo que quiero dejarle claro es que niego la mayor en euskadi se está creando empleo y se está creando empleo

vulnerables que para nosotros como para usted también necesitan nuestra mayor atención esa evolución positiva del empleo está costando mucho esfuerzo y a más y mejor empleo desde más y permanente formación

del mercado y también a la propia economía la situación actual en euskadi es la siguiente en el año dos mil dieciocho la economía vasca tuvo un crecimiento del dos coma ocho por ciento una décima inferior al resultado obtenido el año anterior con dientes de sierra pero al saldo interanual este octubre nos deja siete mil parados el año anterior y en la referencia anual se aprecia una fuerte disminución de las personas paradas de larga duración con un decremento del once coma cinco por ciento

y en este contexto deben interpretarse los resultados puntuales como los del último mes de octubre la economía vasca crece en torno a sus valores potenciales y también está creciendo por encima de lo que son los datos que la unión europea está marcando con unos crecimientos del uno coma cinco por ciento en el ámbito del empleo y en la zona euro del uno coma dos por ciento

en el uno coma seis por ciento en la tasa de empleo si con estos datos usted plantea esa visión negativa de euskadi qué me dirá usted cuando lleguen de verdad las malas épocas euskadi cuenta en este momento con ciento quince mil personas registradas como desempleadas

eso es una cifra importante y preocupante y tenemos que seguir avanzando esta cifra supone menos

el mercado laboral de euskadi está ofreciendo oportunidades y los datos nos dicen que también los colectivos con más dificultades acceden al empleo como le he comentado anteriormente vamos en la buena línea aunque tenemos muchos nubarrones y tenemos que seguir trabajando e insistiendo en esas materias

que tienen que afrontar dificultades con las nuevas situaciones a las que se tienen que enfrentar la digitalización los nuevos empleos y demás entre las personas mayores de cuarenta y cinco años hay dos mil ochocientos sesenta y cinco personas menos en situación de desempleo que en octubre del año dos mil dieciocho

esta evolución muestra cómo la recuperación económica insisto está dando oportunidades a todas las personas nos marcamos como objetivo en esta legislatura

vamos a conseguirlo y estoy seguro que usted también se va a alegrar de ese objetivo conseguido

ha aumentado en el tercer trimestre y se sitúa en el dos por ciento en relación al trimestre

estimaciones que avanza eustat este crecimiento interanual de dos décimas inferior al estimado es dos décimas inferior al estimado por parte del gobierno en el anterior trimestre alemania hoy ha dado datos de crecimiento del pib con un crecimiento de cero coma uno por ciento

en el bundestag alemán qué le diría la señora merkel cuando está crecimiento su economía únicamente al cero coma uno por ciento y en euskadi estamos creciendo al dos por ciento por tanto señor ruiz de arbulo

de cara también al crecimiento del empleo tenemos que seguir avanzando

y para eso estamos implementando políticas para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias pronto culminaremos el actual plan estratégico de empleo

con resultados positivos vamos incorporando también las actualizaciones necesarias para que sea dinámico y responda efectivamente a las necesidades detectadas le repito que el escenario catastrofista que usted pinta en el estado y que atribuye a los cambios de gobierno de madrid nada tiene que ver con nuestro ámbito en euskadi

en nuestro país nuestra ciudadanía su empleo bienestar y avance es nuestro principal objetivo y la recuperación económica sí que está dando oportunidades a todos los colectivos el martes presentaba en la comisión de hacienda el proyecto de presupuestos para el año dos mil veinte las líneas maestras de apoyo al empleo preparadas desde nuestro departamento subrayábamos

se van a dedicar a programas de empleo vamos a reforzar los sistemas y los servicios de fomento y de inserción también estamos adaptando con nuevos programas como le expliqué programa de competencias digitales dirigido al apoyo a la reinserción laboral

también estamos resaltando la creación de programas como el de los bonos de impacto social dirigidos a tender a personas desempleadas de larga duración

una especial consideración o tienen una especial consideración con la perspectiva de género y además abrimos una nueva línea de apoyo a las empresas de inserción

estamos generando nuevas herramientas con objeto de preparar a estas empresas para el futuro y lanbide va a dedicar ciento quince millónes en acciones formativas apostamos por los planes locales de empleo y también estamos poniendo en marcha diferentes iniciativas como pueden ser las zonas de atención prioritaria con más de diez millónes de euros para el dos mil veinte apostamos por tanto con decisión en el ámbito del empleo

ruiz de arbulo no compartimos los negros nubarrones que usted está presentando sí que estamos preocupados en el sentido de que tenemos que estar
a lo que se está produciendo en el exterior pero creemos que euskadi tiene un futuro prometedor eskerrik asko

que yo veo y que he tratado argumentarle con datos absolutamente objetivos por qué nos dijo que no va a cumplir su objetivo de llegar al diez por ciento sí lo hizo en una nota de prensa

los datos de empleo del mes de octubre dijo que veía difícil consolidar el empleo en los tres territorios por debajo del diez por ciento eso es lo que yo he leído en los medios de comunicación que igual leyeron mal la nota y transcribieron otra en cualquier caso

sobre este asunto y sobre este problema porque a pesar de lo que nos ha contado aquí del tercer trimestre señora artolazabal es la peor que hemos tenido en muchos años pero el problema no es que sea la peor que hemos tenido en muchos años es que nosotros vamos en cabeza en muchas cosas tenemos una economía más potente nos castigó menos la crisis y estábamos en una situación de partida muy buena pero es que a mí me daba vergüenza ver en los gráficos de la hoja de la epa en el resumen explicativo

a la cola de todas con los peores compartimientos de ese tercer trimestre que según usted pues debe ser bueno

últimos de empleo no son buenos señora artolazabal es el peor mes de octubre en muchos años en siete o nueve años nos lleva a los tiempos

en todas partes ese es nuestro referente esos datos

combatir ese posible desempleo usted dice que están pendientes de los vaivenes internacionales bien sí

o de las políticas socialistas que todos sabemos que siempre han servido para destruir empleo en este país

todos sabemos por dónde sale el empleo en españa y esa situación se va a consolidar en el tiempo y esa situación económica de las empresas va a hacer que se frene el crecimiento de empleo y se van a destruir

esas dificultades y lo más preocupante es que no hay medidas por parte de su gobierno

para que las empresas incentiven la creación de empleo no existen no las han anunciado no las han previsto se han negado siempre a abrir ese melón no somos atractivos para que vengan nuevas empresas todos sabemos que esos vaivenes internacionales o nacionales han hecho que determinadas zonas de españa especialmente cataluña se muevan muchas empresas

concreto pero creo que no ha venido ninguna se han movido muchas empresas

aquí de las grandes ninguna por algo no somos atractivos algo no está funcionando

no está en sus mejores momentos nacional o extranjera es porque no somos atractivos y así no vamos a crear empleo señora artolazabal

perfectamente y que conoce mejor que yo y no lo puedo negar no son mis opiniones

y veremos en quince días qué es lo que pasa con el mes de noviembre y yo le adelanto señora artolazabal los resultados no van a ser buenos y usted no está poniendo en marcha mecanismos nuevos sigue haciendo lo que estaba haciendo que ha dado malos resultados menos empleo y empleo temporal

nos ha dicho que ha crecido la afiliación qué tipo de afiliados han crecido señora artolazabal los que menos cotizan

y no lo estamos creando señora artolazabal por favor dele una pensada a todo esto y haga algo

y se le ha roto por debajo y al final los pagamos todos los ciudadanos y lo pagan esos ciento quince mil ciudadanos vascos que quieren trabajar y no pueden

que yo ya he cumplido con mi objetivo de gobierno y ese gobierno

objetivo ambicioso y que es difícil pero yo no dije que no lo vamos a cumplir claro que lo vamos a cumplir y estamos empeñados en cumplirlo y además

desempleo registrada en lanbide ya lo siento pero son tendencias positivas en las que están confirmando que las políticas que este gobierno está poniendo en marcha

ambas dos coinciden y la tasa de desempleo en este momento es del nueve coma dos por ciento y por tanto por debajo del diez por ciento que nos habíamos planteado como objetivo

mucho tiempo no me ha gustado mucho cuando ha realizado

en aquel momento los datos de desempleo que daban eran positivos usted retiró esa

cuál iba a ser la respuesta que nosotros le íbamos a dar que yo le iba a dar y en este momento que en octubre los datos de desempleo han sido un poco más

no tan favorables como en aquel momento no ha perdido la oportunidad de meter

la misma interpelación con la misma justificación añadiéndole un parrafito más

podría yo haber mantenido la misma argumentación que en aquel momento tenía preparada y haberle respondido con el corta y pega pero creo señor ruiz de arbulo que me merece un gran respeto el trabajo que los señores parlamentarios y parlamentarias realizan y lo que he hecho ha sido modificar aquella iniciativa

respuesta porque el mercado laboral es cambiante y durante ese tiempo han pasado muchas cosas las medidas para generar empleo como usted sabe

constantemente testándolas y para eso lo que tenemos que hacer es hablar con los agentes implicados y es en lo que estamos hablando con los agentes implicados para saber cuáles son sus necesidades para poder

aquellos recursos que necesitan estamos revisando estamos evaluando estamos estudiando todas las necesidades que el mercado laboral tiene el mundo laboral es un mundo en

no hace falta más que verlo hemos puesto en marcha muchas y nuevas medidas acciones formativas con compromiso de contratación las hemos revisado y hemos visto algunos

que están dando sus resultados acciones locales para promoción del empleo el contrato para el retorno de la educación y también para la formación de los menores de treinta años formación para jóvenes con baja cualificación un nuevo programa que pusimos el año pasado en marcha y cursos de formación también para profesionales en el ámbito de la juventud porque

que tenemos un reto importante que estamos abordando en el empleo de las personas con discapacidad también estamos trabajando de una forma muy intensa y para eso durante los últimos

y yo creo señor ruiz de arbulo que a pesar de que usted no le gusta la situación y que le gustaría igual que fuera de otra forma estamos avanzando y estamos haciendo cosas mire la producción industrial el índice de producción industrial de la comunidad autónoma de euskadi

esas que sí que vienen esas que sí que están invirtiendo en este país esas que sí que están haciendo cosas para dar oportunidades de empleo esas que son las que generan empleo sí que están

el desempleo interanual ha bajado como le decía en el ámbito de las personas mayores de cuarenta y cinco años se han firmado un once por ciento más de contratos firmados de carácter indefinido

hasta junio del dos mil diecinueve en un doce coma veintinueve por ciento y por tanto tenemos

euskadi ha pasado del veintinueve coma nueve por ciento de desempleo juvenil en dos mil doce al diecisiete coma nueve por ciento y la afiliación de la seguridad social en euskadi ha crecido más de un

como le decía señor arbulo seguimos trabajando porque yo no sé cuál es el modelo económico alternativo que usted me propone el que está

consejera consejeras señorías bien esta es una interpelación para obtener información para conocer desde luego desde mi parte desde el desconocimiento científico pero sí desde la preocupación por el desarrollo

hemos hablado en este parlamento de la medicina de precisión de las

que pueden ir implementando sobre las enfermedades en el tratamiento oncológico de nueva generación en los medicamentos innovadores etcétera es decir hay terreno sabemos que hay terreno para avanzar y desde luego las autoridades

nosotros en la prensa especializada estamos haciendo un seguimiento estamos viendo los avances en esta materia en la labor de todo tipo de profesionales médicos oncólogos farmacéuticos hospitalarios etcétera estamos hablando de las terapias

explicaré brevemente aspectos de formación de coordinación de comunicación como ingredientes necesarios en el proceso asistencial ligado

me tiene que hablar desde luego los avances en la medicina de precisión y la adaptación a las características individuales de cada paciente van a ser

de enfermedades graves como es el cáncer dentro de estos avances

terapias avanzadas que se basan en la recopilación modificación de las células inmunes de los pacientes para tratar su propia patología es decir la llegada de estas terapias supone además de una mejora de la calidad y la esperanza de vida de los pacientes un reto

un reto también para la sanidad vasca en este sentido el consenso político que se refleja en iniciativas constructivas es fundamental para seguir construyendo de manera eficiente el desarrollo de la ciencia en nuestro país entre los medicamentos de terapia celular existe una familia llamada de forma genérica

el proceso de fabricación puede ser bajo la norma exención hospitalaria o bien de fabricación

la implantación de estas nuevas terapias requiere un trabajo multidisciplinar entre los diversos departamentos y servicios de los hospitales para su correcta implementación y el desarrollo

modificación y transformación en medicamento de las mismas y una correcta gestión del medicamento obtenido que pasa por la adecuada conservación dispensación administración por eso la importancia de muchos profesionales manejo de los efectos secundarios las terapias concomitantes además hay que considerar en todo momento la importancia de la trazabilidad y fármaco vigilancia del proceso ahí está la agencia europea del medicamento que recomendó las dos primeras

con células car t de fabricación industrial que son

el tratamiento ya está disponible en españa contra dos tipos de cánceres la leucemia

eso hemos conocido y ahí están esos esfuerzos científicos y sanitarios de los profesionales oncólogos el ministerio de sanidad y consumo

también en este sentido aprobó el pasado mes de noviembre el plan de abordaje de las terapias avanzadas en el sistema nacional de salud

garantiza la equidad y especialmente la trazabilidad en este sentido se puede potenciar medidas de eficiencia para poder financiar estas nuevas terapias bien el presente plan el plan tiene como objetivo organizar de forma planificada equitativa segura y eficiente la utilización

en el sistema nacional de salud así como impulsar la investigación pública y la fabricación propia y pública de esos medicamentos en el sistema nacional de salud en unas condiciones que garanticen precisamente lo que todos buscamos estándares de calidad estándares de eficiencia estándares de

en esta línea corresponde y ahí está también el interés de esta cuestión y de que usted nos

los mecanismos y potenciales recursos necesarios para la implementación del plan

de acuerdos innovadores de gestión para poder disponer de estos medicamentos de forma sostenible la aplicación de acuerdos de riesgo compartido en sus diferentes modalidades como el techo de gasto y el pago por resultados estrategias financieras como el pago por obtención

la aplicación de las terapias avanzadas es la última esperanza eso es muy importante es la última esperanza de aquellos pacientes a los que ya solo

destacar que en el caso del cáncer infantil entre el ochenta y el noventa por ciento de los niños con leucemia linfoblástica se curan con quimioterapia intensa o trasplante de médula ósea sin embargo

que no responden a estos tratamientos y ahí estamos avanzando y eso es el elemento fundamental en españa se calcula que cada año se diagnostican unos seiscientos casos

y desde la sociedad española de hematología y hemoterapia describen los tratamientos car como una oportunidad para aquellos pacientes que no responden a los tratamientos

hasta ahora son muy esperanzadores hay un ejemplo la joven

fue la primera niña en recibir esta terapia genética en dos mil doce cuando tenía seis años ahora la joven

entre los menores es del ochenta y tres por ciento cuando se aplican las terapias avanzadas car t son elemento objetivos son ejemplos están ahí es decir están

algo se podrá hacer cuando leemos el plan de las terapias avanzadas pues vemos que la referencia permanente a las comunidades autónomas

a la red de centros de referencia para el uso y administración de los medicamentos car cuando se dice que

autorización sanitaria de funcionamiento y el informe favorable de la comunidad autónoma donde está ubicado de momento parece que aquí

no hay nada de eso porque no hay ningún hospital de referencia en terapias car en la comunidad autónoma vasca el más cercano parece que es valdecilla pero bueno en cualquier caso usted nos explicará por qué no

cada comunidad autónoma solicitará la designación de los centros hospitalarios que considere y se procederá a la valoración del cumplimiento los criterios

designarán esto hasta ahora el país vasco no lo ha hecho ya veremos a ver por dónde

es una cuestión importante también se habla de centros de fabricación propia de medicamentos car estos centros deberán ser identificados propuestos

seguramente algún criterio y algún objetivo y alguna propuesta

de los grupos de trabajo institucional con los representantes de las comunidades autónomas en el seno de esos grupos de trabajo y de esas comisiones en los grupos de expertos donde también las comunidades autónomas pueden nombrar dentro de esa comisión permanente de farmacia

de medicamentos car donde también tienen representantes las comunidades autónomas

de la misma manera y más es decir hay más grupos de expertos en relación con la implementación de lo que este plan

de conocer y de avanzar y de impulsar la acción del gobierno también en relación con algo que está funcionando con algo que da frutos con algo que además ya hospitales

españoles ya se han puesto manos a la obra con ensayos con propuestas

propósitos tiene su departamento en orden a implementar actuaciones en relación con el uso de terapias y medicamentos car

someramente en el momento presupuestario del departamento de salud yo creo que es necesario profundizar ahora estamos fuera de lo que es la implementación de ese plan espero que no estemos fuera de lo que es tomar medidas y trabajar
por la aplicación de las terapias car pero en cualquier caso el gobierno nos lo tendrá que decir muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

sailburuak egun on guztioi en primer lugar señor barrio quiero agradecerle la posibilidad que me brinda a comparecer hoy ante ustedes

los avances que en nuevas terapias de cáncer estamos llevando en euskadi también quiero destacar que valoro su interés en este tipo de nuevas terapias ya que en otras ocasiones a través de preguntas para responder por escrito se ha interesado por las reuniones que estábamos manteniendo respecto a estas terapias con el ministerio de sanidad y por los pasos que estábamos dando

en esta materia entiendo y comparto el interés que le genera este avance terapéutico ya que el futuro del tratamiento del cáncer

estamos ante los primeros pasos de unas nuevas terapias que están cambiando el pronóstico de algunos pacientes afectados por cáncer como ustedes ya saben

en euskadi junto a las enfermedades cardiovasculares el cáncer supone un conjunto de enfermedades de gran impacto

y se estima que cerca de un cuarenta por ciento de las personas recibirá

en los países occidentales como el nuestro pero al mismo tiempo que se incrementa el número de casos nuevos de cáncer el año pasado tuvimos cerca de trece mil quinientos nuevos casos también hay que destacar

y tratamiento lo que significa un aumento de la supervivencia del cáncer así

la tasa de supervivencia estandarizada a los cinco años después del diagnóstico en concreto de aquellos pacientes que fueron

nuevo cáncer en el dos mil doce en euskadi el número estandarizado de supervivientes a cinco años dos mil dieciocho fue

y el cincuenta y nueve coma nueve por ciento en las mujeres una supervivencia superior a la estimada para europa en cinco años y que se encuentra en torno al cinco coma tres por ciento en hombres

cincuenta y ocho por ciento en mujeres en un periodo similar

hay que decir que además de seguir avanzando en todas aquellas nuevas vías que nos permitan un abordaje integral y un tratamiento personalizado seguimos

y los programas de cribado y detección precoz porque constituyen una inversión para alcanzar en condiciones de igualdad mayores niveles de salud para todos

asimismo en la línea de prevención del cáncer y en el marco del plan de salud dos mil trece dos mil veinte tenemos que continuar con la promoción de hábitos saludables de vida

de la alimentación saludable y con las intervenciones sobre alcohol tabaco y otros tóxicos que son necesarias en este contexto quisiera destacar la importante labor que se está llevando a cabo en euskadi también desde la investigación por su relación directa también con las terapias avanzadas

de investigación del sistema sanitario público vasco y su red de investigación donde tenemos más de cuatrocientos proyectos en marcha

para ponernos en contexto y sumándome algunas de las explicaciones que usted ya ha expuesto me gustaría señalar que la terapia con car

para ser utilizada en práctica clínica es decir hasta ahora era de uso exclusivo en pacientes en investigación

se nos presenta hoy en día como un nuevo paradigma de terapia que permite la personalización del tratamiento y en concreto de dos tipos de cáncer como usted ha mencionado

el tipo de cáncer más común entre los menores de veinticinco años con una incidencia de cuatro por cien mil habitantes y que como usted en el momento actual solo se utiliza para aquellos casos refractarios aquellos que han tenido recidiva posterior a terapias de quimioterapia trasplante medular

por tanto son pacientes que están abocados a fallecer habitualmente en edades tempranas de todas formas quiero resaltar

es cierto que se está mejorando e investigando como también ha señalado usted otras terapias car que en lugar de linfocitos t utilicen natural killer y otro

de células que pueden tener esta utilidad y pronto esperemos que sean también útiles para tratar tumores sólidos y otras enfermedades de momento en estos dos tipos de cáncer hematológico que hemos comentado

exclusivamente en aquellos casos quiero resaltar que han tenido recaída son

beneficio y en los que es cierto que en pacientes que están en una etapa avanzada de la enfermedad tienen opciones curativas estos cánceres hematológicos mencionados afectan a los linfocitos

y entre sus responsabilidades las que deben

el defendernos de enfermedades la paradoja es que en estas enfermedades los propios linfocitos están enfermos y no identifican una enfermedad como el cáncer y no son capaces de defendernos de ella

y por lo tanto empiezan estas sin tener algo que las elimine a multiplicarse en nuestro organismo en el caso de una leucemia

de forma mas sintética consiste en extraer sangre del paciente afectado

se reprograman sus linfocitos para volver a ser capaces de luchar contra el cáncer se cultivan estos linfocitos extraídos inicialmente se realiza

y se reintroducen una vez cultivados y con la información genética adecuada al propio paciente y ya estos linfocitos reeducados son en la red sanguínea donde son capaces de reconocer contra las células cancerígenas dicho esto resaltar que se trata de una terapia para el cáncer basado en un nuevo mecanismo de acción no estamos hablando de

la quimioterapia la inmunoterapia o la terapia hormonal es un mecanismo de acción totalmente novedoso con ingeniería genética y

para incorporar información genética a los linfocitos como ven es apasionante conocer

estos tratamientos por lo tanto estamos ante un tratamiento a nivel celular utilizando linfocitos propios del paciente para luchar contra su propio cáncer terapias innovadoras prometedoras que están trasladando del ámbito investigador hasta hace pocos meses

y que precisan profesionales expertos en

los efectos secundarios que pueden generar estas terapias y también aspectos de cultivo ingeniería genética

quiere posicionarse como referente en esta materia como compartirán todos ustedes y para ello siempre garantizando

de los pacientes y los profesionales que vayan a tener contacto con estas terapias de hecho llevamos ya meses trabajando para cumplir los requisitos necesarios

en unidades específicas de centros sanitarios los procedimientos de producción celular son complejos y costosos y requieren de personal altamente cualificado

ha precisado de un plan de abordaje de terapias avanzadas dentro del sistema nacional de salud que usted ha mencionado y hemos participado en estas comisiones desde el punto de vista técnico profesionales de la propia red asistencial

de unos grupos que están trabajando en qué indicaciones en qué medios y en qué unidades y es cierto que el país vasco no ha estado presente

pero bueno tiene cinco minutos para ampliar esa información porque sí que es cierto es más información lo que queremos hemos estado hablando

de lo que era eso usted ha ampliado los detalles pero yo creo que

que tener más información de lo que se está haciendo aquí porque usted dice que quiere posicionarse como referente en esta materia de momento

muchas comunidades autónomas muchos hospitales como referentes de esta materia una amplia lista de hospitales como vall dhebron santa creu joan de déu la fe de valencia

una serie de hospitales que ya están ahí trabajando y que ya han pedido inscribirse autorizarse y trabajar en estas cuestiones

pero parece que hay de momento un poco de retraso ha dicho usted que hay procedimientos complejos y costosos

otras comunidades están decididamente abordándolo desde hace tiempo y lo hemos visto en el plan lo hemos visto en esas comisiones y por eso pensamos y

grupo sabemos que esta es una iniciativa bastante técnica bastante poco

relevante el hecho de incidir y nos estábamos preocupando cómo nos quedábamos atrás en cuestiones que nosotros no sé si hemos liderado pero siempre hemos estado en la cabeza y en la vanguardia o sea que ahora sí que tendrá oportunidad ampliarnos la información de lo que estamos haciendo desde aquí en relación con qué profesionales están participando en euskadi en qué comisiones de expertos se está trabajando esos cuáles son las razones para no haber

de no haber trabajado antes ahora hemos conseguido la información estamos consiguiéndola tenemos que proceder al impulso señora consejera o sea que nosotros como usted entenderá

una iniciativa una moción con un espíritu absolutamente constructivo

hacer que el gobierno desde luego de la mano del parlamento pueda seguir un camino y sobre todo pueda emprender un camino que hasta ahora

como elementos de referencia como instrumentos de trabajo es decir yo creo que hay muchas cuestiones por las que transitar en relación con la garantía del modelo organizativo que todo esto tiene que cambiar la individualización terapéutica sabemos que es una cuestión que tiene su complejidad pero bueno ya se está avanzando y nosotros tenemos que hacerlo lógicamente la dotación económica es fundamental los trámites de los comités de evaluación ahí están tender a cuestiones también socio sanitarias

volveremos a hablar no sé si con usted pero con alguien de su gobierno

para impulsar desde luego la estrategia cart muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

siento haberme quedado sin poder dar la explicación pertinente lo que quiero comentarles es que hemos participado en los comités técnicos que ha habido a nivel del ministerio y en ellos se decidió hacer una serie de convocatorias periódicas inicialmente las primeras convocatorias

de los fármacos concretos que habían sido aprobados por la comisión europea entre otros aspectos por lo que al no haber participado en esos ensayos ha habido no hemos tenido tantas opciones como los centros que usted ha mencionado que por cierto no es uno de ellos por lo tanto hay una serie de convocatorias periódicas a las que tenemos claro que nos vamos a presentar

es cierto que ya le digo que no nos presentamos pero el motivo fue que sabíamos que no se cumplían los requisitos y así en el momento de la presentación

y aparece escrito en actas que el país vasco estaba realizando

opciones a ser elegido entonces como le he mencionado entonces anuncié que era una intención avanzar y el departamento de salud del gobierno vasco ha empezado a desarrollar las acciones necesarias

sea el hospital universitario donostia y que biodonostia coordine la investigación

institutos de investigación la elección de este centro ha sido debida a que el hospital universitario donostia dispone de una unidad de referencia en el país vasco

por lo que tiene el número necesario de casuística que se exige para poder optar a ser centro infusor de estas terapias

uno de los criterios imprescindibles de acreditación por lo tanto llevamos varios meses preparándonos y por ejemplo desde el pasado mes de junio estamos trabajando con el servicio de hematología en la acreditación del programa de trasplante hematopoyético y también con el banco de sangre en el programa de acreditación cat

que antes no cumplíamos y que se nos exige y que ya se han puesto en marcha hay que decir que estos dos requerimientos son importantes para poder ser

que este mismo año se van a iniciar las obras necesarias en el hospital universitario donostia

y que estas obras están contempladas en los presupuestos que les presentamos este pasado martes nuestro objetivo es que en el plazo de un año estas obras hayan finalizado y nos vamos a presentar a la próxima convocatoria con los requisitos que se exigen

para la constitución de una unidad de terapias avanzadas en la osi donostia que tiene como principales características tener una unidad central

y también del instituto de investigación incluyendo servicios y secciones y grupos de investigación también va a tener en este periodo de tiempo que se garantice

que se ha aprobado que son necesarias para estas infusiones hay que señalar que para poder

es necesario que la industria que comercializa estas terapias

así la osi donostialdea tuvo en el mes de julio pasado la primera visita técnica de cualificación del centro por parte de los representantes de estas industrias que comercializan estos cart industriales y que

para el dos mil veintiuno porque cumplamos los requisitos

he hablado de los beneficios pero pueden producir toxicidades de alta complejidad por lo que es necesario también contar con servicios como

para lo que es necesario formar a los profesionales y tener un número mínimo de casos que garantice que todo ello se va a hacer con seguridad además estamos trabajando para el futuro académico con varias iniciativas que nos permitan en un futuro no solo ser infusores sino también productores

gracias señora presidenta señoras consejeras señorías señora consejera le pregunto por una

aprobados por acuerdo de nuestro grupo político con el gobierno y que fue incorporada también en la ley de prórroga presupuestaria para el año dos mil diecinueve también por el acuerdo de nuestro grupo político con el gobierno vasco

cuando la entidad destinataria de la partida se puso en contacto con el departamento allá por marzo dos mil diecinueve la respuesta fue

ustedes se busquen la vida opten a las órdenes del departamento si les cuadran les recuerdo que es una partida que procede de un acuerdo presupuestario porque este gobierno

y para que salgan los presupuestos los proyectos presupuestos en este caso

los administrados debemos cumplir las leyes el gobierno ejerce su voluntad

nunca tuvieron interés en la promoción turístico comercial para los mercados y nunca incluyeron ninguna partida para este tipo de promoción ahora la han incluido para el año dos mil veinte

pasado el tiempo y llegado primeros de noviembre nada de nada

tuvieron una llamada del basque allá hace tiempo que no recuerdan muy bien algunos sí que el basque tampoco tenía mucho conocimiento de qué iba a ser programa y algunos de los mercados

que la llamada era no concretaba nada y que otros explicaron que las acciones que les proponían tenían difícil encaje en su espacio

tanto la bretxa como la ribera han pedido reunión con la dirección de comercio y no se les ha atendido

por qué no participan o parece que no iban a participar la semana pasada no sé qué ha pasado estos días en la ribera vitoria y la bretxa

para cada mercado qué acciones se van a desarrollar cuándo

cuándo han comunicado este programa a los mercados qué planificación tienen para esta promoción y en qué mercados eskerrik asko

efectivamente en el caso del mercado de abastos de vitoria este departamento ha colaborado en proyectos de dinamización concretos como la puesta en marcha de la página web o el programa de visitas guiadas

en dos mil diecinueve le recuerdo presupuesto prorrogado no hubo acuerdo simplemente es un presupuesto prorrogado no hay obligación de ejecutar la partida presupuestaria hemos venido hablando de esta partida en varias ocasiones como usted ha mencionado

ceñidas a un solo mercado sino a todos los mercados

consideramos a los mercados tradicionales como un elemento indispensable para la articulación comercial de nuestras ciudades y nuestros pueblos por eso efectivamente en este ejercicio dos mil diecinueve

vamos a desarrollar una serie de acciones de promoción y de dinamización

en programa de actividades y promoción en los mercados de abastos llamados merkatutik sukaldera

realizaremos una serie de talleres de cocinas y showcockings en los mercados de las tres capitales pero también en otros mercados emblemáticos de otras localidades como puedan ser portugalete

por tanto como le decía desde el departamento consideramos a los mercados de abastos uno de nuestros grandes recursos comerciales y turísticos por lo que es importante

en tan solo uno de ellos es vital para su supervivencia fortalecerlos como marca con acciones coordinadas y sobre todo sostenidas en el tiempo por eso además de estas acciones concretas de dinamización también les puedo anunciar que los mercados desde el próximo ejercicio estarán incluidos en las bases de la orden precisamente de emprendimiento

de producto euskadi gastronómica con las posibilidades de trabajo en red y de promoción que esto conlleva por tanto las acciones no son ni una son varias es un conjunto de varias de ellas acciones
a desarrollar en el tiempo y no solo en un mercado sino en la totalidad de los mercados que como le decía son veinticinco en bizkaia eskerrik asko eskerrik asko

fantástica y que lo amplíen a toda euskadi nos parece muy bien pero yo le he preguntado por la campaña que van a anunciar mañana y que no han comunicado a los mercados hoy no tienen conocimiento

de noviembre le parece normal no es normal no es normal y cada mercado tiene sus programaciones sabe usted a qué se dedican los mercados sabe a qué se dedican es imposible que encaje probablemente todas las acciones que ustedes han programado me puede decir

gracias presidenta obviamente los mercados están informados como le comentaba mañana presentamos

está toda la programación todos los mercados todos los cocineros obviamente un proyecto de esta naturaleza

y mañana como les decía tenemos el lujo de ponerlo en marcha

hacer un llamamiento no solo a los propios mercados y comerciantes sino a la ciudadanía en general porque va a ser un evento en el que podrán disfrutar además

anteriormente pero que es muy importante para nosotros y es que también dentro del pilotaje del producto turismo de compra responsable en euskadi que vamos a desplegar con la omt también vamos a incluir a los mercados de abastos

un análisis diagnóstico de la situación de cada uno de los mercados porque las realidades son muy dispares uno de otro y con eso tratamos de trabajar y dirigir las acciones y las políticas concretas adecuándonos a la realidad de cada uno de ellos por lo tanto

tradicionales el primer contacto con el consumidor con el comercio local y sobre todo con el producto local y también nuestros propios agricultores muchas gracias eskerrik asko eskerrik asko

el mes de octubre que dice del registro de empresas y actividades turísticas de euskadi difícilmente se puede intuir que en el objeto del decreto también está incluida la regulación por primera vez de los guías turísticas de euskadi un hito podríamos decir una regulación tan demandada por el sector

en el enunciado del decreto señora consejera por qué esta falta de transparencia ante un hecho casi histórico en esta comunidad autónoma en dos mil diecinueve regulado por

nos parece que merece una especial atención no sé si usted lo sabe pero por si acaso lo cuento cuando se elaboró la ley de turismo aprobada y tramitada en el año dos mil seis

no se contó con el sector de guías de turismo de euskadi para la redacción especialmente del título quinto de la actividad turística del artículo sesenta y cuatro de guías de turismo el sector mostró su malestar y se les dijo que lo importante es el reglamento y ahí participaréis pues tampoco tampoco se les ha llamado para el reglamento para la elaboración de este proyecto de decreto proyecto de decreto

y que se entera el sector de este decreto por un artículo en prensa euskadi regulará por primera vez la actividad de los guías turísticos esto hizo saltar las alarmas del sector y rápidamente se pusieron a trabajar para poder presentar alegaciones al proyecto

es cierto que a punto de finalizar el plazo de disposición pública se avisa desde el gobierno a la oficina de turismo

y pregunto yo qué tiene que ver este tema con la oficina de turismo el gobierno vasco tiene el listado de los guías de turismo una vía directa de contacto y realmente es difícil de entender los métodos que utilizan señora consejera por qué no se ha contado con el sector en todo este proceso qué criterios van a aplicar a la hora de atender las alegaciones

cree usted señora consejera que este proyecto decreto cumple con el compromiso adquirido por todas las comunidades autónomas y el ministerio para armonizar en lo posible la normativa autonómica en la materia de guías de turismo y garantizar unos mínimos que garanticen la unidad de mercado cómo se van a habilitar aquellos guías quienes con anterioridad a la entrada en vigor del decreto hayan venido ejerciendo la actividad

en la pasada legislatura efectivamente se aprobó la ley de turismo la cual indica que la

excepto en aquellos elementos que se integran dentro del patrimonio cultural del país vasco para los cuales sí será necesaria la habilitación

el plazo para recibir las aportaciones de la ciudadanía ha finalizado el veintinueve de octubre pero esto es un proceso de consulta pública previo al procedimiento

se han presentado más de una decena de aportaciones que lógicamente serán estudiadas de cara a la elaboración de dicho decreto asimismo el veintiséis de noviembre es decir veintiséis de este mes

precisamente para recibir sus aportaciones a esta decreto analizadas todas ellas seguiremos con la orden de inicio

de decreto como digo para establecer el contenido de este primer texto se tendrán en cuenta obviamente punto de vista del sector como no puede ser de otra manera y el estudio de la normativa autonómica actualmente vigente el procedimiento de elaboración del decreto implica una fase nueva de audiencia pública y la comunicación del texto a las entidades representativas de los guías de turismo para que tanto ellas como cualquier otra persona interesada

individualmente por tanto el objetivo es un marco regulatorio que permita el desarrollo de la profesión que lo haga con garantías tanto para el profesional que lo desempeña como para el usuario del servicio gracias

nosotros creemos que es el momento la oportunidad de hacer una regulación que ponga nuestras guías en igualdad de condiciones con los guías foráneos que vienen aquí de otras comunidades autónomas o de otros países que nos visiten tenemos un personal en el sector de guías muy valioso que aporta calidad al turismo por ello llevan los años que llevan sino no serían demandados y no estarían ahí es muy importante cuidarlo y mantenerlo nos sorprende que en el proyecto que en este inicio de documento llámelo como quiera pero que tenían que haber estado consultadas no se pueden enterar de esto por un titular de periódico

relegadas cuando se llevó a cabo el proyecto de ley y el desarrollo de la ley y creemos que hay que tenerles en cuenta porque como le digo yo

señora consejera hay que hacer un proyecto donde haya una definición clara de qué queremos conseguir cómo va a ser el ejercicio de la profesión la calidad del servicio las habilitaciones reconocimiento profesional las obligaciones el régimen sancionador para aquel que no cumpla hay una serie de condiciones que hay que ponerlas claras y el documento que ustedes han presentado

las guías es que ni figura por lo tanto creo que me parece bien que reconduzcan esta situación

y que siga los decretos como otras comunidades autónomas yo he mirado solo comunidades socialistas no he mirado otras y desde luego nada que ver con lo que ustedes han

señora lópez de ocariz es que no es una cuestión de reconducir nada

lo que pasa es que ahora el procedimiento nos obliga a hacer que está bien que además debe ser así una consulta pública previa al inicio de cualquier procedimiento estamos precisamente en la fase en la que hay que hablar con el sector y estamos hablando con el sector

convocada con todos los representantes del sector con lo cual no se ha empezado a hacer nada que no se cuente con el sector

es un decreto al final donde lo que tenemos que poner es en valor la figura del guía habilitado y para ello bueno pues se ha comenzado a abordar esta reglamentación que venía determinada

y lo haremos de la mano del sector como no puede ser de otra forma ni con cualquier otro procedimiento eskerrik asko eskerrik asko

señora beltrán de heredia como usted ya sabe la empresa araluce de igorre pertenece al grupo batz de mondragón

y actualmente pasa por dificultades para su continuidad sus ciento cuarenta y uno trabajadores y trabajadoras y la comarca de arratia tienen encima la amenaza de la liquidación de la empresa

la amenaza del despido y el desempleo los trabajadores y trabajadoras piden aplazar el cierre para conseguir inversores o la recolocación en otras compañías de la cooperativa

y se movilizaron pero la dirección rechaza esas soluciones quiere imponer el cierre reduciendo carga de trabajo y tratando de retirar productos y activos no solo eso

se presentaron en el centro de trabajo con una comunicación de cierre de las instalaciones el pasado ocho de noviembre y de madrugada en esa intervención

y maquinaria como denuncian los sindicatos mientras los trabajadores trataban de impedirlo un despliegue desproporcionado que continuó a la mañana siguiente ante la presencia de los trabajadores que intentaban defender sus puestos de trabajo señora beltrán de heredia cómo justifica la actuación de la ertzaintza y la de su departamento en este contexto

conflicto de este problema de viabilidad empresarial de estas cuestiones contractuales y de las relaciones laborales en donde subyace la cuestión de este

no sé yo si usted o su grupo pueden o tienen alguna posibilidad de resolver este conflicto de intervenir para ayudar en la solución de los problemas que ha planteado empresa y los trabajadores implicados pero lo que sí le puedo asegurar es que el departamento de seguridad

tienen competencias en esta materia y desde luego no tienen posibilidades

de acceder a dar una solución a este problema lo único que hizo la ertzaintza ese ocho de noviembre en igorre

la presencia de la ertzaintza y las doce aproximadamente del mediodía del día siguiente

una salida para aquella situación que se había provocado fue evitar insisto evitar que se produjeran problemas de seguridad problemas de enfrentamiento y problemas de orden público ese es el único motivo y la única intervención que tuvo

el día ocho de noviembre en igorre evitar que el conflicto

de las partes implicadas derivaran hacia enfrentamientos que pudieran terminar en un problema de orden público eskerrik asko

yo le hago las preguntas y usted la que tiene que justificar una actuación que a todas luces sí fue desproporcionada como decía

que según ustedes estaba cerrada la empresa no estaba cerrada

y el derecho a la huelga que permiten el acceso de representantes de los trabajadores a las instalaciones la ley incluso el código penal impiden actuaciones que provoquen la descapitalización ilegal de una empresa que pueda perjudicar los derechos laborales pero es que además de todo esto

no se justifica es ilegal según los sindicatos

decidieron acompañar a la empresa y no a las trabajadoras hay otra cuestión que no acabamos de entender y es su nula coordinación con el departamento de trabajo

cuando su departamento y la ertzaintza acompañan las acciones de la empresa el departamento de trabajo

y en cambio esa decisión empresarial pone en peligro la continuidad de la actividad si se retiran bienes o se altera el funcionamiento de la maquinaria suponemos que el mismo tipo de coordinación habrá tenido con el departamento de la señora tapia con su política industrial en defensa de la industria

en defender los intereses de una parte los de la patronal una dirección empresarial perteneciente a un grupo

y por otro lado no se defienden los derechos de las trabajadoras y trabajadores de los sindicatos del pueblo de igorre y de la comarca de arratia que está sufriendo un chantaje constante con la amenaza del cierre

beltrán de heredia instrumentos legales que avalan una actuación diferente a la que se llevó a cabo el ocho de noviembre por su departamento no tiene ninguna excusa con esto

derechos que están siendo amenazados y que su vulneración son delitos y deben ser protegidos

como responsable máxima nos preguntamos si su departamento actuaría de la misma forma si supongamos un colectivo de trabajadoras o un sindicato llama a la ertzaintza para que evite una descapitalización por salida ilegal de bienes de una empresa

contra acreedores y trabajadores o bien si se cometen acciones de sabotaje contra maquinaria provocados por una empresa para justificar su cierre

la ertzaintza debería estar para proteger los derechos de todas y el ocho de noviembre señora beltrán de heredia no fue así eskerrik asko

señora garcía ha tenido usted ocasión de escuchar a la consejera

ha trabajado y está trabajando y seguirá trabajando en acciones y soluciones viables en este caso en estos conflictos y en otros que existen pero insisto está usted confundida no es competencia de este departamento

ni tomar partido por ninguna de las partes implicadas en la defensa de los derechos laborales económicos societarios internos o externos de ninguna empresa no es cometido de la ertzaintza tomar parte lo que le corresponde

y libertades de todas y cada una de las personas en el caso de conflicto en este caso por los derechos y libertades de todas las personas implicadas

de un posible conflicto entre trabajadores y responsables de la empresa hizo lo que le correspondía hacer es decir acudir allí

unos dispositivos para ver cómo estaba la situación in situ

mantenerse en esa posición de vigilancia de prevención y de intervención para evitar cualquier tipo de conflicto de

eskubidea ere bermatuz hori beti defendiendo los derechos y libertades de todas y cada una de las personas

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi señor estarrona entiendo que me dirige

sino como miembro del gobierno vasco además me interpela sobre si comparto el contenido de un decreto ley aprobado por el gobierno de españa

de la posible confusión que se puede dar al tomar una parte como el todo la argumentación y contenido del decreto ley es muy amplio y parte de una constatación como es la amenaza que supone para los derechos y seguridad de la ciudadanía la ilegítima utilización de las nuevas tecnologías concretamente se pretende garantizar

tanto en las relaciones entre las distintas administraciones públicas cuando traten datos personales como entre ciudadanos y administraciones públicas cuando las últimas proceden a la recopilación tratamiento y almacenamiento de datos personales en ejercicio de una función pública señoría espero que usted comparta al igual que yo el objetivo del decreto ley

y los míos y los de las personas a las que representamos no sean utilizados arbitrariamente por las administraciones públicas y que tampoco lo hagan todas las empresas

que así como el dinero no debe estar en los paraísos fiscales que nuestros datos no sean manipulados y utilizados para lo que no está previsto desde paraísos digitales además el real decreto ley contempla como no podía ser de otra manera intervenir en el caso de que alguien que sea administración empresa o particular pretenda

intervención siempre sometida a la tutela judicial este es el verdadero y amplio sentido del decreto ley al que usted se refiere eskerrik asko

claro que comparto señora consejera muchas de las cuestiones que usted aquí ha enumerado pero lo que no comparto es que todo esto se pueda hacer sin una orden judicial previa y que lo pueda hacer directamente el gobierno porque esto

de excepción que se aprobó a un mes de los atentados del once de septiembre del dos mil uno en los estados unidos

se utilizaba como pretexto para dar amplios poderes al ejecutivo en aquella ocasión pero sin

estados unidos que fue muy criticada por los estamentos internacionales pero que le sirvió al presidente bush en aquel entonces el amigo de la guerra de aznar ahora que se habla tanto de la aznarización de la política para hacer y deshacer como le dio la gana

cosas llevó a cabo saltándose por encima todos los derechos civiles políticos y humanos fundamentales pues bien el gobierno en funciones del partido socialista de su partido en plena campaña electoral a cinco días de las elecciones y saltándose el trámite de control parlamentario ha puesto en marcha un artefacto legal que recuerda demasiado a la patriot act

de opinión de participación política que están preservados en el derecho internacional algo escandaloso y que es más propio de países cuyos gobiernos tienen caracteres claramente totalitarios pero esto no es más que un síntoma más un síntoma más consecuencia de la grave

el estado una constatación más de la recentralización e involución en términos democráticos y otra evidencia más de la anomalía democrática que vive el reino de españa y que

son medidas de carácter coercitivo y totalitario o neototalitario como hoy planteaba y esta misma mañana hablaba

es seguir ahondando en el autogobierno y desarrollo de nuestras competencias pues bien en este decreto además este decreto tiene ese añadido y es que estamos

un gobierno vasco en este caso en el cual haya partidos que tomen este tipo de medidas coercitivas que vayan en contra de los derechos fundamentales y civiles y políticos más básicos

señor estarrona creo que está cayendo en el error del que le prevenía en mi primera intervención

de este decreto ley desde una perspectiva reduccionista y cargada de apriorismos y juicios de valor que no se sostienen con un análisis más exhaustivo

sean utilizados de forma fraudulenta usted ya ha decidido que se van a cerrar web sin justificación usted ya ha sentenciado que el decreto va en contra de iniciativas que pudieran tomarse

pues bien en mi opinión si el gobierno de esa autonomía pretendiera utilizar los datos de los ciudadanos y ciudadanas que obran en su poder con fines no previstos es decir fraudulentos efectivamente las disposiciones contenidas en el decreto ley lo impedirían lo mismo si la ultraderecha tuviera acceso a esos datos personales a los suyos a los míos y los utilizara para la selección ideológica política por origen o raza

en lo que no voy a entrar señor estarrona es en votaciones que correspondan a otras instancias como es el congreso de los diputados y es el posicionamiento que el congreso de los diputados tendrá

presentarse yo me quedo con lo que tiene mayor importancia

impedir que mis datos los suyos y los de todas las personas sean utilizados de forma fraudulenta invito a que lo analice desde esta perspectiva y seguro que compartiremos el verdadero valor del real decreto ley catorce barra dos mil diecinueve de treinta y uno de octubre eskerrik asko